hace aguas por todos los lados y ya les décimos que los ricos cada día son más ricos y los pobres cada vez más pobres y los jóvenes al no tener nada dependemos de nuestras familias porque este modelo de bienestar enormemente familiarista

o sus madres porque para este sistema la juventud y sobre todo la juventud de dieciocho

aquellos que mayoritariamente no suelen ser empleados no son productivos por lo tanto no son ni sujetos de derecho hitzeman ziguten horrengandik urrun

se piensa en los jóvenes pensando en peter pan como si el momento actual no importase como si vivir con veintitrés años como cuando tenías catorce fuese algo normal nos decís a ver jóvenes tranquilidad ya creceréis y ya veréis lo que cuesta la vida como si no nos diesemos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor

de analizar y decidir por nosotras mismas o el comentario despectivo

perdona nosotros no queremos vuestros huevos nosotros queremos decidir lo que comemos

hacerlo y sin pedir permiso absolutamente a nadie no somos unas niñas no somos unas crías y estamos realmente hartas y agotadas de tener que depender

e instituciones que nos dejan siempre al margen de todas las decisiones que nos afectan eta horren aurrean eta horren aurrean erabaki dugu gaurkoan

un aporte maravilloso hacia la juventud titular de propaganda además la que nos disteis el lunes pero en ese titular y en ese artículo también se comentaban los datos y esos datos reflejan claramente

este programa para la emancipación desde los dieciocho a los veinticinco ya que la edad media de los beneficiarios se sitúa en los veintinueve y los menores de veinticinco son solamente el ocho por ciento explíqueme por favor qué clase de efectividad es esta porque a mí de verdad que no me salen las cuentas

a los treinta cómo es posible que no sea válida una política específica de vivienda para los jóvenes durante la mitad de la juventud

su discurso no me deja indiferente porque yo también he tenido dieciocho años y también he querido y he tenido ese sentimiento de querer emanciparme de querer tener todo de querer tener un sueldo fijo de irme de casa pronto

y mis padres siguen mandando mucho no no tengo cuarenta llegaré dentro de poco a los cuarenta

que se tiene de joven que se sigue teniendo de mayor y que siempre incluso emocionalmente dependeremos de nuestros padres pero esto simplemente es un matiz el tema de la emancipación en los jóvenes es un problema que viene de muy atrás lo tuvimos nosotros los de mi generación para emanciparnos cuando

a día de hoy el paro juvenil de entre dieciséis y veintinueve años estos son datos del eustat

al entorno del diez por ciento del resto esto genera un sentimiento de impotencia hoy y lo generaba antes

ahora le sumamos a esa tasa de paro las dificultades de encontrar trabajo en pandemia y claro

pero salieron nuestros abuelos saldremos nosotros y saldrán los jóvenes de ahora porque esa fuerza

pero nosotros también tenemos la obligación de animar a nuestros jóvenes

un futuro cambiante que siempre ha sido cambiante y que genera miedos pero

ahora nos toca echar un cable pero la pregunta es es la manera adecuada ayudarles ofreciéndole la emancipación por el mero hecho de ser jóvenes y no por el mero hecho de tener

una madurez que necesitamos simplemente por el hecho de emanciparse creo que tenemos que darle la vuelta

al sistema de viviendas de alquiler social para que funcionen en equidad

porque si no se generan injusticias e insatisfacciones pero nosotros

el problema es un acceso a la vivienda a las viviendas de alquiler social ya no solo

de ganas de ilusión pero hay que saber con madurez y reflexionar cuál es la situación

nos toca abrir el melón y reestructurar el sistema de ayudas vasco y es que no se trata de repartir por doquier sino de impulsar con un objetivo concreto en el caso de los jóvenes para que se vean respaldados e ilusionados en el esfuerzo de conseguir su desarrollo de vida

que tengan hijos y que consigamos invertir la pirámide poblacional y tener un futuro esperanzador nosotros no vamos a apoyar su iniciativa la moción de bildu

porque simplemente habla de un proyecto piloto pero piloto para qué cuál es su futuro qué queremos hacer de ese proyecto en qué queremos que derive y además voy a decir una cosa que está muy dicha y muy usada pero se trata de dar la caña y

y no podemos dejar de escuchar las voces de los jóvenes claro que no nos queda claro que necesitan un impulso

reformemos la estructura de ayudas del país vasco y generemos impulsos y no perfiles de personas que se aboquen a la cronificación en el sistema de ayudas solo puedo decir que entiendo la problemática de los jóvenes entendemos desde aquí el impulso que tienen los jóvenes pero

cuando uno se echa a volar puede caerse

hay que hacer un recorrido y ese recorrido se hace creciendo con los años por eso cuando décimos cuando seas mayor te darás cuenta de que no era tan grave de que vas a conseguir lo que quieres si tienes y ganas de esfuerzo por lo tanto no se trata de una ayuda puntual sino se trata de un impulso con un objetivo concreto al futuro para una sociedad mejor de futuro con unos

se ha dicho antes con unos trabajos adecuados y con unos salarios adecuados que permitan desarrollarse

una vida adecuada y justa para todos gracias eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos

eskerrik asko egun on guztioi mientras estoy hablando en este momento centenares de trabajadores y trabajadoras acaban de salir de aiaraldea de camino a gasteiz y mañana llegarán a este parlamento son trabajadores y trabajadoras de tubacex

como representantes de la clase trabajadora que son y no con un dispositivo policial que para nada tapará

ziurtasunak ematea cuando hablamos de la situación de la juventud podemos hablar de la realidad material obviamente esa realidad material moldea la situación personal la situación mental y la situación de bienestar

el problema es previo a la covid sin embargo en estudios como por ejemplo

nos sorprende que la moción más generalizada durante el confinamiento de los jóvenes es que digan que habéis sentido perdón la emoción más generalizada que los jóvenes digan haber sentido durante el confinamiento el ochenta y cinco por ciento de los encuestados

por delante del aburrimiento o del estrés del momento y las preocupaciones básicas son los estudios y el trabajo en el cuarenta y uno por ciento de los jóvenes

de bienestar mediterráneo donde tan importante es la familia pero ese colchón

piensa que para nada va a trabajar de lo suyo de lo que se ha formado que el setenta por ciento de los contratos de menores de treinta y cinco años son temporales

general si la precariedad es vital

especialmente lo es en la clase trabajadora joven una clase trabajadora joven que tiene nombres y apellidos además tiene el nombre de joven pero sí tienen los apellidos de mujer migrante y esto se traduce ya se ha dicho que si la edad ideal para emanciparse son los veinticuatro y la media europea es veintiséis en euskadi es treinta treinta años seis años de diferencia entre la situación ideal y la situación real y eso es un absoluto

en el periodo de vida probablemente más vivo que tiene una persona últimamente además se está manoseando excesivamente el concepto de libertad libertad

con sueldos y condiciones dignas con derecho a acceder a una vivienda digna que no suponga como supone en euskadi para las personas jóvenes destinar más del cincuenta y cinco por ciento de los ingresos al pago de la misma por tanto la libertad son condiciones materiales de trabajo

gauzak egin daiteke es fundamental reforzar los servicios públicos y en especial

en el mercado de trabajo acabar de una vez por todas con las últimas reformas laborales y sus aspectos más lesivos es fundamental seguir con reconocimientos como por ejemplo el derecho laboral de los riders riders que generalmente no solo pero generalmente son gente

realizado por el diálogo social liderado por la ministra yolanda díaz es fundamental

del gobierno vasco y los planes de empleo juvenil son importantes pero no son suficientes menos aun cuando ocultan en muchos casos situaciones de alta pero además es fundamental reforzar la política pública de vivienda la que tenemos aquí en euskadi reforzar el presupuesto del departamento aprobar de una vez por todas los decretos que están pendientes construir y rehabilitar más vivienda pública de alquiler aumentar

de los presupuestos y hace poco este pleno votó en su contra y también mejorar gaztelagun que además tendremos una iniciativa dentro de unas semanas para debatir sobre ello y algunas de las medidas que anunció la semana pasada el consejero

de reforzarlas decía el consejero en la respuesta a la interpelación que es importante hacer política constante y coherente y nosotros décimos que estamos

y más presupuesto y sabe que para eso puede contar con nuestro grupo

cosa que es fundamental además de todo esto que estamos hablando y permítame que insista es necesaria la regulación de los precios del mercado privado

de vivienda y la satisfacción de derechos siempre

una medida esta la regulación de precios de alquiler que se ha puesto en marcha en muchísimos países de europa y que está demostrando junto a otras políticas igual que aquí lo quiero dejar de nuevo

es una más pero una de las más importantes para eso que tanto usamos todos y todas de no dejar a nadie atrás es una medida del todo imprescindible una opinión además que coincide con nueve de cada diez jóvenes en la consulta pública que hizo el injuve sobre el plan estatal de la agenda dos mil treinta nueve de cada diez jóvenes estaban respaldando la regulación

junto a estas que hemos descrito hay toda una amalgama de políticas que seguramente todos los grupos estamos trabajando en las enmiendas a la ley de juventud pero toca

akordio akordioari es importante avanzar

y en ese sentido una renta de emancipación un proyecto piloto que es de lo que estamos hablando en el día de hoy puede ser puede ser una buena herramienta para dotar de un futuro digno a la juventud

un acicate más para garantizar el bienestar de las personas de las personas jóvenes en este caso hemezortzi hogeita hiru urte bitarteko gazteen

un ejemplo cercano en el ayuntamiento de barcelona no con una renta de emancipación pero sí con una renta básica de ciudadanía el proyecto b mincome

es momento de reforzar la política de vivienda desde

iniciativas en ese sentido es momento de regular los precios del alquiler es momento de poner freno a la precariedad y en esa lucha todas las herramientas son imprescindibles y este proyecto piloto puede ser un buen análisis una buena prueba de políticas innovadoras que vayan a redundar en el beneficio
al final de la calidad de vida de la gente joven en euskadi eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi tengo que reconocer que leyendo los términos de la moción

primeramente porque no define nada más allá de que se desarrolle un programa novedoso en forma de renta básica para la emancipación

dieciocho y veintitrés años nada más ni en qué condiciones ni con qué requisitos nada

en fin y yo qué quiere que le diga fiar las políticas del gobierno

decidir en determinadas asambleas de determinadas asociaciones de jóvenes y colectivos que seguramente

desearía no me parece algo verdaderamente eficiente en fin si me permite la ironía y tirando de la rae define juventud como

período de la vida humana que precede inmediatamente a la madurez atendiendo a esta segunda acepción ya le puedo asegurar

peter pan en la vida los socialistas vascos lo que tenemos muy claro es que dos de los pilares fundamentales en la emancipación juvenil son en primer lugar

somos precisamente los socialistas los que lideramos esas materias en las figuras de la vicelehendakari idoia mendia y el consejero arriola hoy aquí presente y sí se lo digo sin ambages los socialistas apostamos por gaztelagun

un programa pionero este sí y lo pusimos en marcha nosotros los socialistas y aunque ya no es único porque cuando algo funciona se intenta copiar ya han sido varias las comunidades autónomas las que han tomado este programa como ejemplo

y sorteo nosotros tenemos una convocatoria abierta y continuada para que ningún joven tenga que competir con otro porque eso no es una ayuda eso es una lotería y nosotros queremos fiar el futuro de nuestros jóvenes a garantías y no a azares

ha conseguido un efecto multiplicador en euskadi desde su puesta en marcha

de municipios vascos han desarrollado sus propias ayudas a la emancipación juvenil y todas casualmente con las mismas cuantías máximas de ayuda que establece

con la intención de apoyar la emancipación juvenil a través de prestaciones económicas para el pago del alquiler y surgió porque entendemos que buena parte de la juventud quedaba en muchas ocasiones fuera del sistema social de alquiler por el hecho de tener trabajo

de cargas familiares remediar esta situación que nosotros consideramos que es injusta a todas luces

durante tres años consecutivos fue precisamente el origen del programa

en apenas dos años de vida ha ayudado ya a más de dos mil trescientos jóvenes que además cuentan con otras herramientas para acceder a una vivienda

y como consecuencia de ello ha ajustado sus requisitos en su primer año de vida mejorando sustancialmente sus resultados en una coyuntura especialmente difícil como la que estamos

han logrado incrementar en un ciento veintisiete por ciento las personas beneficiarias durante el año dos mil veinte

por otra parte en breve es deseo de este gobierno aprobar una orden de medidas financieras de aplicación para este año dos mil veintiuno que entre otras cuestiones

sesenta y cinco euros en las tres capitales bilbao donostia

y los seiscientos sesenta y cinco euros en el resto de municipios

y necesidad de vivienda en euskadi dos mil diecinueve señala que la mayoría de los jóvenes que viven de alquiler pagan rentas que oscilan entre los cuatrocientos cincuenta y uno euros

euros mensuales con una media que se sitúa en los seiscientos quince euros al mes lo comentamos aquí porque ya son varias las iniciativas parlamentarias de diverso tipo

incluso el señor martínez lo ha mencionado en su intervención unas cuantías que no son elegidos al azar sino que están referenciadas en

que proporciona los precios reales de los contratos de arrendamiento vigentes en cada municipio

setecientos cuarenta y dos en bilbao y setecientos doce en gasteiz evidentemente hay barrios que están por encima de esas medias y otros que se sitúan

tampoco la cuantía de la ayuda es casual en un tramo más alto coincide con la destinada en la prestación complementaria de vivienda y en la prestación económica de vivienda doscientos cincuenta euros mensuales

es decir guarda una coherencia con el resto de ayudas dependientes del gobierno vasco destinadas al pago del alquiler de vivienda y parece lógico que sea así

que un o una joven disfrute de una ayuda igual pero no superior a las recibidas por las personas con derecho subjetivo a la vivienda reconocido a partir del año dos mil veintidós será una línea subvencional permanente asociada y vinculada coherentemente al conjunto de prestaciones al alquiler

y facilitar la emancipación de los y las jóvenes en euskadi como por ejemplo el establecimiento de un cupo específico de viviendas protegidas para jóvenes el impulso a proyectos innovadores de vivienda colaborativa el desarrollo de otras fórmulas y medidas orientadas a facilitar el alquiler juvenil pero como le decía eso también tiene que llevar aparejada la necesidad de poner en práctica políticas eficientes

de empleo los socialistas desde luego que apostamos por el empleo juvenil como por ejemplo queda demostrado con el programa reactívate un plan que se presentó hace apenas un mes y al que el departamento de trabajo y empleo va a dedicar un importante esfuerzo para unir a empresas y a jóvenes posibilitándoles una experiencia profesional a aquellos que no la tengan un proyecto que va a facilitar que doscientos jóvenes puedan este año adquirir la experiencia profesional

que así lo exige reactívate por ejemplo está pensado para aquellos y aquellas que a pesar de su formación no pueden acreditar experiencia y en ese sentido es en ese bucle el que se debe romper porque lo necesitan quienes buscan empleo pero también las empresas

por delante se trata además de que ese empleo sea de calidad indudablemente porque es una de las condiciones para la calidad es la estabilidad y ese

juvenil este es un programa que se suma a los ya existentes en materia de empleo juvenil tampoco se queda única y exclusivamente la política de este gobierno en este programa que acaba de presentar y que otros programas otras políticas tienen como objetivo la adecuación de la formación a la demanda laboral el refuerzo de las políticas de formación dual

el control de la calidad y la durabilidad de los contratos de las personas jóvenes el impulso a la contratación de jóvenes con experiencia el fortalecimiento de las becas de formación el fomento de oportunidades en el mercado laboral en sectores estratégicos para euskadi

el impulso al emprendizaje para proyectos diseñados para jóvenes políticas específicas para la inserción laboral

en definitiva una amalgama muy amplia de políticas que lo que persiguen es acabar con el desempleo juvenil y posibilitar también dando ese paso

emanciparse como podrán observar los socialistas no proponemos hacemos sin necesidad de tutelajes por iniciativa propia

para la juventud vasca políticas que no solo faciliten la emancipación sino su desarrollo personal mucho más allá de rentas básicas construyendo país sociedad valores y haciendo de nuestra juventud un colectivo activo

añadido para nuestra sociedad eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

por lo tanto teniendo en cuenta como he dicho que las dificultades para la emancipación juvenil no son un problema derivado estrictamente del covid sino que la pandemia lo que ha hecho es

para todos los colectivos vulnerables dicho sea de paso no solo para los y las jóvenes consideramos que deben buscarse soluciones estructurales y transversales

otras de corto y medio plazo sin hacer creer a la juventud que existen fórmulas mágicas e inmediatas para solucionarlo prácticamente todo

del problema existente en la emancipación juvenil ya tiene previstas distintas medidas para favorecer el acceso de la juventud a una vivienda digna y asequible

son cinco los ejes de actuación integrados en el programa de gobierno dos mil veinte dos mil veinticuatro para el acceso a la vivienda de las personas jóvenes acciones que necesariamente

del departamento de igualdad justicia y políticas sociales y que considero que es importante al menos recordar cuáles son desarrollar

establecer una reserva preferente de vivienda protegida en régimen de alquiler poner en marcha alternativas innovadoras para el acceso a la vivienda juvenil

orientar los alojamientos dotacionales al colectivo joven y abordar proyectos piloto para facilitar viviendas juveniles como las cooperativas de cesión de uso

además como ya he mencionado existen en el programa de gobierno distintas áreas de actuación aparte del programa gaztelagun

iniciativas por parte del gobierno vasco que creo que son pioneras y que ayudarán a que los y las jóvenes puedan obtener una vivienda digna

en políticas de vivienda y emancipación porque las soluciones de todos los problemas parece que

es una prestación o es un programa que no será universal jamás

no existen por eso hemos traído justamente un proyecto piloto un proyecto piloto que es básicamente poner encima de la mesa un proyecto de futuro que podemos llevar a cabo planteándolo en

y que luego sacaremos conclusiones y veremos si es efectivo no gu

decíais que gaztelagun bueno puede llegar a solucionar

pero se ve claramente que no y además se ve claramente que la sociedad gizartea jendartea gazteak eskatzen ari direla beste aukera batzuk

y de oportunidades que la gran libertad y la gran oportunidad que pueden tener los jóvenes es tener un trabajo adecuado que les lleve a poder conseguir una vivienda o un alquiler dentro

crean que se están creando para jóvenes pero no una renta básica un café para todos la gran oportunidad que tenemos que intentar trabajar para los jóvenes es que puedan tener la oportunidad de encontrar la libertad de encontrar el trabajo

que sea adecuado para que los jóvenes puedan emanciparse en unas condiciones adecuadas para crear un futuro de vida halagüeño es decir un futuro de vida

nosotros nada en el concepto de un café para todos una renta básica para todos para ayudarles a emanciparse sino vamos a intentar trabajar en el fondo de la cuestión y el fondo de la cuestión es que no hay un mercado de oportunidades laborales para los jóvenes porque también hay que reconocer

no tenemos un trabajo fijo para toda la vida es que cuando uno empieza tiene que trabajar y labrarse un futuro trabajo fijo

con una demostración de capacidad esfuerzo y con una demostración de los conocimientos adquiridos

querido hacer de verdad no creo que sea ustedes se centran en unas ayudas para la emancipación y yo creo que es otra la idea existen unos programas que hay que mejorar pero no es la idea la de dar un café para todos para que

encontrar una calidad de vida y una calidad laboral para que puedan hacerlo en mejores condiciones

llegue a eso están los programas gaztelagun están

responder a la totalidad de la demanda que hay que cumpla con las condiciones con los requisitos que se exigen y además el gobierno vasco discrimina positivamente a los jóvenes en las ayudas para el pago del alquiler y eso es una política concreta eso no es que la traiga gaztelagun es que son políticas concretas que favorecen la emancipación de

a mí me surgen una serie de preguntas ustedes han lanzado aquí algo

sin concretar nada por qué de dieciocho a veintitrés años qué datos tienen ustedes que les indiquen que los jóvenes entre dieciocho a veintitrés

de deseo de emancipación altísimos para concretar y no alargarlo yo qué sé de dieciocho a veintiocho o a treinta años por qué de dieciocho

por qué no políticas que generen otro tipo de sinergias por qué no apostar por el desarrollo personal con políticas que favorezcan que mejoren la formación el empleo

por qué una renta esa es la pregunta por qué una renta y por qué no otro tipo de políticas concretas que hagan posible que además

puedan desarrollarse mejor personalmente por qué no

hacer políticas proactivas en beneficio de la juventud no darles una renta básica una renta básica por qué una renta universal para cualquier joven sin establecer ningún tipo de condición ningún tipo de requisito por qué no por ejemplo y aunque a usted le pueda parecer paternalista por qué no en función de la renta de sus

dónde está la equidad dónde está la justicia por qué hay jóvenes que tienen una vida acomodada que pueden acceder a esa renta y no otras personas otros jóvenes que tienen verdaderas necesidades por qué no establecen prioridades por qué una renta básica

por qué esa es mi pregunta dónde queda la equidad dónde queda la justicia dónde queda el establecimiento de una serie de requisitos que precisamente pueden hacer de esa renta algo justo por qué traen ustedes aquí algo así a boleo a bote pronto que se les acaba de ocurrir diciendo que lo defienden una serie de asociaciones traigan una propuesta concreta trabájensela

en fin pero traigan algo concreto no digan una renta universal para cualquier joven para que pueda emanciparse

ni pies ni cabeza en fin yo creo que hay aquí muchísimas cuestiones que pueden definirse que pueden establecerse que pueden hablarse en fin traer una iniciativa de este tipo sin trabajársela en absoluto me parece cuando menos

porque ha sido una iniciativa pionera no la que usted nos propone que por cierto hubo un gobierno en españa

y que la coyuntura política en este país hizo que un señor que se llamaba mariano rajoy la hiciera decaer ya hubo algo parecido

ni tan siquiera similar me atrevería a decirle ni tan siquiera similar pero nosotros apostamos por poner en práctica políticas concretas nosotros no traemos

nosotros traemos como le he mencionado entre otras más de veinte políticas concretas que favorecen

a este país para que aporten a esta sociedad pero sobre todo para que esta sociedad

hacer política y no traer aquí divagaciones en forma de rentas básicas sin definir que no dicen absolutamente nada más que darle a usted la oportunidad

el que os entienda que os compre eskerrik asko eskerrik asko

día de la república en multitud de ciudades de euskadi se celebró el noventa aniversario de la proclamación de la

ayer en nuestros pueblos se reconocía el papel fundamental que jugó la

el papel de ser el primer régimen democrático que ha conocido nuestro pueblo el papel de ser el régimen que modernizó un país atrasado

corrupta caduca y decrépita estatu kolpearen aurrean demokrazia defendatu zutenei

zirenei omenaldia egiteko aukera dela uste dugu porque ayer se defendía también el sacrificio y las vidas cercenadas de quienes defendieron la república contra la que se alzó la bestia fascista en mil novecientos treinta y seis

sufriría toda europa mujeres y hombres que ayer reivindicaban una sociedad identificada

la igualdad los derechos humanos y la justicia social valores y principios que se implementaron por primera vez en nuestro país con el régimen democrático

república y no con otro más allá de algunas declaraciones

el gobierno vasco no ha hecho un reconocimiento explícito a esta cuestión

al lehendakari le instaba a que se hiciera con actos y acciones concretas por parte del gobierno vasco solicitud que parece haber caído en saco roto el gobierno vasco no parece dispuesto a poner en valor el importante papel de la a través de ningún tipo de actuación concreta en su noventa aniversario es una mala noticia el gobierno vasco no ha estado

república es cierto que ayer el lehendakari

en una breve nota la intención de su gobierno de sumarse a una posible celebración o declaración de reconocimiento por parte de este parlamento al papel de aquella república lamentablemente y de manera contradictoria

el propio partido del lehendakari el partido nacionalista vasco uno de los actores que hoy parece que va a imposibilitar que ese reconocimiento al valor de la

adelante en este parlamento y lo lamentamos profundamente

la tercera república pero también

o incluso muchos de quienes quieren una república vasca independiente también entre quienes ayer reconocieron el papel de la

muchas y muchos de los que hoy no cuestionan aún abiertamente el régimen monárquico en el que vivimos en la actualidad personas

república y la necesidad de no olvidar y que defienden por lo tanto la importancia de que se reconozca el papel de la

y a quienes la defendieron cuatro ideas políticas distintas que coinciden

de las cuatro fuerzas que más apoyo popular recibimos en las últimas elecciones vascas sobre esa base y desde el conocimiento de nuestras

desde elkarrekin podemos izquierda unida hemos traído una propuesta de moción para que el parlamento vasco haga dignidad a la historia de nuestro pueblo y reconozca la trascendencia de la

desgraciadamente el sectarismo se ha impuesto y los dos grupos mayoritarios de la cámara van a impedir que este parlamento haga el reconocimiento público de primer orden que la y quienes la defendieron se merecen yo hoy venía dispuesto a confrontar

popular y vox fuerzas que nunca van a reconocer el primer modelo democrático que existió en su país por muy españoles que ellos se creen que son

pero no necesitábamos ni necesitamos sus votos para que este parlamento reconozca el papel que la

de nuestro pueblo han sido desgraciadamente el partido nacionalista vasco y euskal herria bildu quienes han cerrado la puerta al reconocimiento y puesta en valor de la segundo república por parte del parlamento vasco en el noventa

que además tuvo como saben ustedes protagonismo vasco con eibar a la cabeza de los municipios que la reconocieron el argumento

ha sido anteponer su propio modelo no al modelo de los demás

en base a la correlación de fuerzas si mi grupo hubiera traído una iniciativa hablando de nuestro modelo la tercera república lo que han hecho

al reconocimiento del papel jugado por una república que ya no existe porque fue aniquilada por la violencia fascista precisamente por ser aquello que deberíamos reconocer un régimen democrático y legítimo

sustentadas en una monarquía corrupta y despótica

a sus postulados políticos entre otras cosas porque yo no voy a renunciar jamás a los míos y defenderé la tercera república hasta su proclamación o hasta mi último

no implica la renuncia a ninguno de los anhelos y planteamientos de las cuatro fuerzas mayoritarias de esta cámara el reconocimiento a la

a nuestra historia y hoy tengo que lamentar que el partido nacionalista vasco y euskal herria bildu han decidido dar la espalda a la historia del pueblo vasco

juega un papel trascendental y un punto de inflexión con la

llegaron los derechos para las y los trabajadores por primera vez derechos para la mujer la educación pública la protección social la cultura dejó de ser un privilegio y llegó a las masas populares por primera vez toda una larga lista de avances

y todo ello en una república que apenas tuvo tiempo de florecer porque el golpe y el levantamiento de la reacción se dio cuando la joven república

en poco más de lo que hoy dura una legislatura los cambios que sufrió el país fueron radicales y radicalmente positivos especialmente si atendemos al breve periodo de tiempo del que hablamos no reconocer esto

no reconocer esto es darle la espalda a nuestra historia y el parlamento vasco no debería dar la espalda a la historia de nuestro pueblo

que no dudaron ni un segundo en jugarse la vida para intentar detener la sublevación ilegal e ilegítima

contra la república miles de ellos lo pagaron con su vida

en su piel con sus huesos helados en fríos penales y campos de concentración con la persecución y con la humillación yo lo conozco muy bien

el partido comunista fueron cientos de miles quienes sufrieron la matanza y la persecución

por defender el estatuto por defender al gobierno vasco por defender la democracia

durante cuarenta años de guerra cárceles

tampoco era el modelo ideal de mis camaradas en los años treinta ni lo es hoy en día yo pertenezco a un partido que aspira al socialismo y al comunismo y la

no era eso pero defendieron la legalidad democrática

principios y valores y lo hicieron además con gentes pertenecientes a otras corrientes políticas de las que hoy estas cuatro fuerzas a las que me he referido son y somos herederas

a quienes sacamos ahora de fosas en nuestras montañas les hubiera gustado saber que hoy tantos años después un parlamento vasco que ellos no llegaron a conocer

al régimen republicano noventa años después nosotras vamos a seguir luchando por la tercera república pero no estamos dispuestas a olvidar

y lo que supuso para nuestro pueblo y no lo estamos porque sería una injusticia con el pasado pero sobre todo un grave error

porque hoy después de mucho tiempo volvemos a mirar a la cara a la extrema derecha y al fascismo en las instituciones de todo el estado y también en las de euskadi

y en el reconocimiento de aquella república sobre la que ellos vierten sus mentiras para deslegitimarla ante la opinión pública desde mil novecientos treinta y nueve

es un ejercicio de memoria democrática de primer orden para este país no hacerlo supone en nuestra opinión un ejercicio de desmemoria que insistimos es injusto injusto también

e injusto con nuestra historia desde nuestro grupo vamos a hacer honor a la memoria de la

pero también con los votos de todas aquellas y aquellos que quieran hoy después de escucharnos compartir un reconocimiento institucional de primer orden a la

sobre la cual también yo sé que los diferentes grupos tienen

sus matices las republicanas y republicanos vascos saben que pueden contar con nosotras

para defender la memoria democrática de nuestro pueblo

podremos ponernos de acuerdo en el futuro democrático de euskadi si no somos tan siquiera capaces de reconocer conjuntamente el valor de la

en nuestra historia democrática nosotras no olvidamos nosotras no renunciamos a la tercero república pero no olvidamos la

por eso hoy quiero hacer nuestro el mensaje de los comunistas vascos

en boca de jesús larrañaga goierri fusilado en mil novecientos cuarenta y dos gora euskadi askatuta viva españa libre gora

buenos días gracias presidenta consejero señorías bien señor hernández yo no voy a criticar

su idealización el mito con el que usted trata la

un modelo en el que nadie creía señor hernández un modelo el que nadie creía y que algunos

sea que en ese sentido yo prefiero

para ello valorar el régimen democrático que disfrutamos ahora y que en comparación con lo que usted nos propone nos estimula a mi grupo

como ciudadanos como demócratas como personas y con la experiencia además que hemos tenido

yo podría por supuesto valorar algunas cuestiones que sucedieron entonces más ligadas

de mil novecientos treinta y uno pero a mí desde luego me sería

imposible ensalzar un régimen de nueve años con tanta

con tanta convulsión con tanta inseguridad con golpes de estado interno con despropósitos políticos electorales institucionales

en todos sus momentos y en todas sus fases y en todos sus gobiernos por eso nuestra enmienda de totalidad quiere ser algo más fresco que esa parte de la historia que tuvo muchas luces pero la mayoría fueron

distinto hemos comparado y hemos tenido

ha servido a nuestras libertades en estos cuarenta y tres años cuarenta y tres años

nueve años pues desde luego no aguantan una comparación de totalidad dice que el parlamento vasco reivindica los valores de democracia defensa de las libertades igualdad justicia respeto a los derechos humanos y ciudadanos así como el valor del estado social y democrático de derecho que sin precedentes

consecuencia de la evolución política de la historia de españa y de todos sus antecedentes

algunos pueden estar por ahí instalados pero la constitución del setenta y ocho culminó verdaderamente un proceso en el que poco

república no me cabe ninguna duda que la evolución de este régimen el que tenemos ahora el de la constitución del setenta y ocho

tendrá como consecuencia no lo que usted vaticina tendrá como consecuencia su mejora su inclusión

su desarrollo el avance en políticas de todo tipo la definitiva unión europea que preserva también esa capacidad que en este momento nos engrandece y fortalece desde luego eso es lo que tendrá como desarrollo

tuvo como consecuencia golpes de estado interno una guerra civil una dictadura cuál es la pregunta señor hernández qué se hizo tan mal para dividir a la sociedad española por la mitad

tan letal eso es lo que se tendría que preguntar usted quiero que sirva mi intervención en este punto para vuelvo a decir para valorar ensalzar el régimen de libertades de que dispone españa desde la aprobación de la constitución de mil novecientos setenta y ocho algo que con la no se produjo en absoluto y no quiero menospreciar

menospreciar pero en comparación con el periodo de desarrollo y de paz

cuarenta y tres años vive desde la instauración de la monarquía constitucional en el setenta y ocho

república niveles de desarrollo económico social e institucional y cívico con los que hemos dispuesto en el régimen político actual en la monarquía constitucional

no fue capaz de impedir de neutralizar un golpe de estado no fue capaz la constitución del setenta y ocho

de impedir de neutralizar un golpe de estado y de recuperarse con mucho más vigor y eso lo hemos vivido la mayoría de los que estamos aquí lo conseguido por la república

se ha multiplicado por mil en lo que se refiere a democracia a desarrollo institucional con el régimen con la constitución de mil novecientos setenta y ocho y con la monarquía constitucional

la república no pudo más que ir produciendo un inquietante proceso de descomposición de descomposición en la convivencia de las tierras de españa eso produjo los gobiernos de la segundo república debilitamiento zozobra

crisis institucional violencia golpes de estado descomposición de los partidos actuación de los partidos en contra de otros

algunos querían traer a españa el modelo

querían quitar a azaña de los suyos para poner el modelo la dictadura del proletariado imagínese usted qué ejemplo

fundamento ideológico tenía todo eso en relación con lo que hablaban algunos lamentablemente el enconamiento y el odio

fruto de ineptitudes políticas y de actitudes hostiles

en el proceder de los distintos gobiernos republicanos incapaces de dar a la sociedad nada incapaces de dar a la sociedad un gobierno tranquilo de desarrollo un sosiego democrático promover un sistema efectivo de libertades y de convivencia fracasaron estrepitosamente

ser incapaces de neutralizar de impedir de no conseguir que los

o sea que en ese sentido también fue una lección de historia de la que hemos aprendido y desde luego hemos aprendido que eso nunca

y creo que tenemos los mimbres que tenemos el andamiaje perfecto para que eso

mirar hacia adelante mirar

reales de los ciudadanos que no son los del recuerdo de la

en las cámaras en las que podamos participar los problemas reales de los ciudadanos a cambiar las cosas para bien a tratar de crear conflictos de interpretación que tratar de crear conflictos de interpretación de la historia como tratan estas cuestiones como las que usted nos trae nos trae

esto será la institución de la monarquía o será la religión

o sea que en ese sentido nosotros nos concentraremos más a mi grupo le importa más mirar hacia adelante dedicar nuestro tiempo a solucionar los problemas graves de los ciudadanos entender que tenemos un régimen de libertades

sin precedentes fruto de muchas partes de nuestra historia y desde luego yo lo que sí que creo es que hoy no sé si va a fracasar usted en su afán de celebrar la segundo república en esta cámara usted ha dicho que es posible que

lo que usted pretende celebrar la república pero mire usted no sé lo que pasará al final

con su iniciativa consigue algo peor como pretende alguna enmienda muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

y ahora también seguimos como hace noventa años con un ejército que amenaza con un golpe de estado noventa años después

noventa años después las naciones del estado seguimos sin ser reconocidas noventa años después no tenemos derecho de autodeterminación tamalez

señor hernández nos habla de reconocer la historia nosotras le hablamos de hacer historia precisamente por respeto a quienes dieron su vida

bide hori egin bakarrik batera egin behar dugu bide hori sin unidad nunca conseguiremos la república vasca el otro día en el aberri eguna un vasco de argentina me decía que desde allí pues

de forma unitaria luego se disculpó diciendo pues que quizás pecaba de ingenuidad le contesté que no era ingenuidad

sino que esa era nuestra razón de ser y entonces me envió un conocido

sean unidos esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devorarán

a veces desde lejos se ve todo mucho más claro siempre agradeceré a la diáspora vasca

porque buena parte de nuestra diáspora es descendiente de aquellos que tuvieron que exiliarse por la guerra y el franquismo son los hijos y las hijas los nietos y las nietas de gudaris de nacionalistas de abertzales de republicanos de aquellos

otro remedio que seguir viviendo humilladas con miedo solas de aquellas que supieron organizarse dentro y fuera de la cárcel aquellas que empezaron ya entonces con la cultura de las visitas a los presos noventa años después aquí seguimos

los ejercicios de historia ficción que he escuchado

o bueno o la reinterpretación o la interpretación de parte escuchada también en la intervención del señor barrio del partido popular ciudadanos sí que me gustaría centrar un poco el debate llevándolo un poco a lo más elevado me gustaría centrar el debate en aquello que para los socialistas representa la

quisiera hablar de los valores republicanos del republicanismo cívico

que para la mayoría de la especie humana y durante decenas de millares de años la idea de que la humanidad incluye a todo ser humano sobre la faz de la tierra no existe en absoluto

pierde sentido más allá de los límites de cada tribu de cada grupo lingüístico y a veces incluso de una simple aldea y no crean sus señorías que

de la melanesia nada más lejos de la realidad los discursos que se basaron en esa visión excluyente de la tribu del imperio de la nación fueron germen de la mayor barbarie y sinrazón que ha conocido la humanidad

el mundo se vio sumido en una guerra total desde mil novecientos catorce y hasta mil novecientos cuarenta y cinco los imperios los fascismos las dictaduras

y la difusión del odio hacia el otro arrastraron a millónes y millónes de personas

y es en este contexto en esta noche de la triste historia del siglo veinte donde podemos encontrar

de odio y destrucción primero la república de weimar en alemania y luego años después la

española por cierto ambas experiencias con importante protagonismo de los partidos socialistas

o por el franquismo español finalmente germinaría años después experiencias por tanto como la

fueron pequeñas semillas plantadas en un mundo que parecía empeñado absolutamente en autodestruirse el socialista julián besteiro

en el discurso de aprobación de la constitución de mil novecientos treinta y uno advertía de la situación de oasis en la que creían vivir los españoles yo llamo la atención decía

a medida que se van haciendo penetrables los desiertos no tienen valor

desafortunadamente su profecía terminó por cumplirse en julio de mil novecientos treinta y seis

la semilla sin embargo estaba plantada y los metros y metros de arena vertida por la tiranía fascista de franco no lograría ahogarla con la muerte del dictador en mil novecientos setenta y cinco los frutos volverían a brotar

volverían a aflorar por tanto este debate el debate

y sus valores o aquello que representa no es un debate sobre un episodio coyuntural una anécdota de la historia estamos hablando de una semilla

terminaría por germinar por toda europa a partir de mil novecientos cuarenta y cinco los jóvenes de aquella época cuando alzaron la cabeza

la necesidad del acuerdo del pacto entre diferentes de la necesidad de reconocer al prójimo como parte de un proyecto universal

y por encima de estado naciones y banderas asumir que todo ser humano forma parte de algo común al que llamamos humanidad

haciendo un paseo por la historia pero en estos tiempos donde los mensajes de ciento cuarenta caracteres y sobre todo los discursos que manosean obscenamente la historia sin otro objetivo

he considerado absolutamente necesario buscar las raíces de lo que los socialistas entendemos por valores republicanos porque la democracia

la hermandad no son leyes otorgadas por ningún dios no siempre existieron y por ello siempre estamos en peligro de que nos las intenten arrebatar se trata de valores

dieron la vida en lo ancho y largo de todo el mundo son valores

sudor y lágrimas conquistar me gustaría por todo ello reivindicar los valores republicanos ensalzar ese republicanismo cívico del que tanto le gusta hablar a mi buen amigo mikel unzalu

medible concreta de mejorar la calidad de nuestras democracias de recuperar la confianza en la política un republicanismo cívico que reivindica el triunfo de la voluntad popular de la democracia

porque en una sociedad republicana es el reconocimiento del diferente y el respeto por las reglas políticas y de convivencia lo que nos hace ciudadanos

ni la identidad ni la lengua ni la religión ni las tradiciones ni las creencias de cada uno importan para ser ciudadanos

u otros la república es todo lo contrario

es una forma de convivencia política cívica y por supuesto

ni precisamente el modelo en que se designa al jefe del estado por cierto creo ver

en las palabras del señor lehendakari cuando no hace tanto tiempo aquí en esta misma cámara nos hablaba de la necesidad de republicanizar la política y me alegro sinceramente de escucharle porque ese es el camino por el que venimos transitando los socialistas desde hace ya más de ciento cuarenta años porque el partido socialista tiene una clara trayectoria

y los derechos ciudadanos los socialistas hemos defendido estos valores durante la dictadura de primo de rivera durante la segundo república durante la tiranía fascista de franco

partícipes de la transición de la vuelta a la democracia y naturalmente de la constitución de mil novecientos setenta y ocho con la que estamos absolutamente comprometidos

y nosotros los socialistas vascos hoy aquí desde esta cámara lo reafirmamos que sin socialismo

ha sido así y así seguirá siendo creo que en esta intervención han quedado sobradamente explicados los fundamentos de nuestra enmienda a la iniciativa del grupo elkarrekin podemos izquierda unida ir más allá

para ir al reconocimiento de los valores republicanos que subyacen detrás en todo momento hemos intentado poner en práctica

hablando hoy aquí el valor del diálogo entre diferentes y el de la voluntad de acuerdo un acuerdo entre las partes que no supone la cesión de ninguna de ellas la victoria del conjunto no ha sido posible

no queremos alimentar un debate cuya crónica bien se podría haber escrito de víspera todos y todas sabemos sabíamos lo que íbamos a decir cada uno de los grupos hoy aquí en este debate

para finalizar agradecer el esfuerzo realizado al señor egibar y especialmente al señor hernández

ha impedido el acuerdo cuando dos no llegan a un acuerdo está claro que la responsabilidad es a repartir entre ambas partes lamento desde luego

en lugar de poner el foco en aquello que nos une desde luego mi grupo lo que sí hará será abstenerse en la votación de la iniciativa presentada

jon hernández no han utilizado un argumento sino un subterfugio no creo que sea verdad

una versión incompleta después hay otra serie de versiones con las que no voy a entrar

la república es la responsable del glorioso alzamiento y de la guerra civil sin comentarios sin comentarios pero

es de con la perspectiva de noventa años actualizar posicionamientos no caer en un debate

tal y como se ha citado aquí en alguna de las participaciones el lehendakari en la contestación a su interpelación le decía le contestaba mejor servicio homenaje que podemos hacer a los valores y principios republicanos era desde la acción política institucional

esa serie de materias tanto en el orden social o en el orden de la participación

desde la administración pública desde el gobierno vasco desde las distintas instituciones y yo creo que cuando

uno de sus primeros puntos que todavía ayer a la noche yo le decía estaría dispuesto a entrar en ese punto si

y hacemos una versión completa de la radiografía que unos y otros tenemos de lo que sucedió en la república ese periodo tan corto de cinco años pero que tuvo una relevancia todavía superior los primeros seis meses por ejemplo en lo que se refiere al tema vasco

pero cuando nosotros décimos que expresamos el compromiso en su caso del parlamento con los principios del republicanismo basados en valores democráticos

desde luego estamos completando completando lo que debe ser la arquitectura de cualquier estado que se precie democrático

como en la forma de resolver los conflictos este es el anclaje que tenemos nosotros con los valores del republicanismo pero les decía que había que acompañar en el tema territorial porque podemos hablar de los valores y principios de la constitución del treinta y uno de la

y podemos hablar de regionalismo y podemos hablar de cuál fue el devenir de los distintos

de configuración de una realidad diferente

y ahí si nos atenemos al calendario

se proclama la república pero tres días después el diecisiete o sea datorren larunbatean

josé antonio aguirrek proclama

después de firmar el manifiesto dice el reconocimiento a la república y exige el reconocimiento del principio del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco

cuya constitución y leyes serán desarrolladas sin demora en virtud del natural e inalienable

el tantas veces interesadamente venerado josé antonio aguirre decía esto bien

que es mes y medio después dieciocho alcaldes de álava bizkaia gipuzkoa y navarra

para unificar los esfuerzos para la consecución del estatuto vasco porque había la previsión de unas elecciones a cortes constituyentes

entonces se hace esa asamblea magna de alcaldes vascos de los cuatro territorios se reúnen y aprueban un texto

el catorce de junio y se aprueba el proyecto por cuatrocientos veintisiete alcaldes a favor de un total de quinientos cuarenta y ocho casi el ochenta por ciento de los alcaldes y esa iniciativa se traslada nuevamente a los responsables de la república y evidentemente la resultante de esa gestión

se le dice nuevamente no además se alega la inconstitucionalidad inconstitucionalidad del proyecto

estatuto del estado vasco pero con una relación de competencias y una relación también compartida con lo que podían ser los poderes de la república

que fue promulgada el nueve de diciembre del treinta y uno ya es tratada de inconstitucional al parecer el recurso preventivo el

hay otro intento también resulta fallido y el estatuto que se consigue evidentemente es

en octubre del treinta y seis y con una duración de nueve meses en guerra gobierno constituido

que se suele decir como timbre de prestigio

de otra manera concentración de todas las formaciones políticas salvo los sublevados ese era el escenario en el que se fijó la posición política de todos aquellos alcaldes sobre dos bases

que en el debate sobre el rey emérito también salió

república vasca confederada con las demás repúblicas ibéricas y soberanía plena de euskadi sobre sí misma desde el ejercicio del derecho de autodeterminación

oinarria eta hori zen yo le preguntaba y le decía si hacemos un esfuerzo todos pues podemos complementar esa

de una moneda o de una misma moneda pero en todo caso para que las dos cuestiones pudieran actuar en simbiosis reconocimiento de valores republicanos y también entre ellos

el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación que configura una realidad política soberana por otra parte porque claro se habla de república república klaro errepublika izaerak

la de la revolución la de liberté fraternité y égalité joan den astean konturatu dira

hoy podemos nos trae aquí una nueva historia de buenos y malos

de todo o nada es su forma de hacer política ocultar o ignorar los grises que es precisamente donde se desarrolla la vida de las personas

buenos izquierda buena frente a derecha mala hombres malos frente a mujeres buenas monarquía

buena ese siempre es su juego llegando incluso a animar y jalear la presión y el ataque a sus malos particulares desde hace unos meses nosotros los de vox en este caso concreto su bueno indiscutible es la segundo república el noventa aniversario de la misma

es decir nada pero les viene muy bien para mantener viva su particular cruzada contra lo que denominan de forma evidentemente despectiva el régimen del setenta y ocho

y que desde el propio gobierno dinamite las estructuras que definen y sostienen nuestra nación cada reconocimiento de la

de nuestra democracia es su forma de hacer política crear enemigos

de la multiculturalidad de las mujeres ejemplos incuestionables del compromiso del buen hacer responsabilidad y lo peor es que saben que mienten cuando hacen esta distinción que incendian las calles que se aprovechan de la necesidad y el hartazgo de tantas personas pero lo necesitan para crecer para crecer como partido bueno antes les servía para crecer porque hoy su futuro es más bien oscuro por no decir aquí en euskadi morir engullidos por bildu en españa desaparecer víctimas de la arrogancia de su líder el macho alfa

en materia económica fueron sensiblemente peores que los previos y la convulsión política fue la tónica general combinando en el año treinta y cuatro

fueron años de revueltas anarquistas de asesinatos también de conservadores de frustración y de crispación eso es lo que hacían

la manipulación de la historia para adecuarla a sus particulares intereses

entre confrontación barata entre rojos y azules maniqueísmo nefasto que ya no les beneficia ni a ustedes y de ahí que se empeñen en azuzar el guerracivilismo en soliviantar a sus seguidores persigan y agredan a quienes desde vox se enfrentan a sus obsesiones comunistas

y hoy está más presente que nunca gracias a su partido en las calles lo vimos en vallecas en la que su gente gritaba moriréis como en el treinta y seis

la historia es historia con mayúsculas y no memoria histórica porque la memoria histórica es subjetiva y manipulable porque nos aleja de la ciencia y de la objetividad

para que conmemore aquello que buenamente crea necesario conmemorar

a no tener que escuchar a políticos de medio pelo diciéndonos lo que es bueno y lo que es malo

sí y dejen de perseguir con violencia las ideas les vimos en vallecas también les vimos en la campaña electoral catalana y en las vascas por supuesto

que la que ustedes animan contra nosotros todas son violencias señores de podemos

demostrado por último acabaré diciéndoles que ustedes mencionan mucho a clara campoamor

muy bonito la revolución española vista por una republicana para que conozcan bien las crueldades que narra de primera mano de comunistas y socialistas en la

el señor carmelo barrio hoy acusa a nuestra moción

un conflicto de interpretación de la historia es curioso cuando el relato que ha realizado usted y desde luego por supuesto la señora martínez representante de vox el relato sobre la segundo república que han planteado coincide básicamente con el relato

franquista aquel relato que se preocupaba

a un sistema democrático y legítimo con todas sus contradicciones y fallas como cualquier otro y en un momento convulso de la historia en europa

de aquello que cometieron quienes se sublevaron contra la legalidad curiosamente nuestra moción que no es muy profusa que no es un relato histórico es una moción pequeña concreta coincide con la versión

tanto españoles vascos como extranjeros de lo que supuso la

a más detalles porque efectivamente luego hay muchas cuestiones e interpretaciones sobre muchas cosas que pasaron

salvar el núcleo en el día de hoy al que usted ha hecho referencia era simplemente hacer un reconocimiento por parte de este parlamento a la como primer régimen democrático que vivió el pueblo vasco con todas sus contradicciones con todas sus

con todos los relatos que usted ha contado y con otros que tampoco nos llenan de orgullo a nuestra coalición tanto en euskadi como en el conjunto del estado

se nos habla de que es una iniciativa nostálgica idealizadora y no es cierto es mentira decía la señora agirre

pero lo tenemos que cambiar con memoria sin memoria no lo podemos cambiar y reconocer lo que supuso la

anteriormente es un ejercicio de memoria que merecía el pueblo vasco por parte de su parlamento es verdad

una monarquía que usted ha descrito señora aguirre en noviembre pasado ya trajimos nuestro grupo una iniciativa

cuál es nuestra alternativa yo lo he dicho claramente yo sé cuál es mi alternativa a futuro y no deslegitimo la de ningún otro ya entonces aprobamos

su grupo y el nuestro una iniciativa de rechazo a la actual monarquía que no salió en esta cámara porque precisamente hay visiones diferentes sobre cómo tenemos que construir nuestro futuro

sobre cómo tenemos que construir nuestro futuro cuando quieran nosotros estamos dispuestos a debatir cómo tenemos que construir nuestro futuro

en la ponencia de autogobierno pero este era un debate mucho más sencillo mucho más necesario era simplemente hacer justicia

en euskadi hacerla justicia desde un mínimo común denominador que yo creo que podíamos haber tenido

más cercanos a la sensibilidad del partido nacionalista vasco

sí están dispuestos a hacer es ese reconocimiento

república no vamos a construir un futuro sin mirar al pasado no se trata

todas y todos miramos siempre a nuestro pasado si queremos construir el futuro

es que este parlamento hiciera ese reconocimiento y yo tengo que lamentar que no haya sido posible porque

había una mayoría parlamentaria suficiente para ello porque ya sabemos la interpretación de vox y del partido popular señor egibar ya sabíamos

yo no coincido con el representante del partido socialista de que todos sabíamos lo que íbamos a decir porque yo no sabía lo que iba a decir hasta no saber la posición de las fuerzas políticas pero sí sabía lo que iba a decir la derecha española heredera de aquel

y no hemos sido capaces el resto de fuerzas democráticas de unirnos en un mínimo común para hoy en día donde aquellos

vuelven a estar muy presentes en el estado español y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para hacer un mínimo reconocimiento a lo que supuso la

levantamiento nos parecía absolutamente necesario en estos momentos que nos hubiéramos podido poner de acuerdo y otro día

el futuro político de nuestro pueblo cuestión sobre la que yo jamás voy a renunciar a discutir también besterik ez

gracias presidenta señor hernández

igual y además siempre igual siempre igual en estas cuestiones

lo que a usted no le gusta estas cuestiones

a lo que usted no le gusta le llama franquismo insulta a mi grupo diciéndonos que somos los herederos de no sé qué cuando usted sabe que eso absolutamente incierto es mentira y yo se lo he dicho aquí en relación con el análisis que he hecho del final de la segundo república de la causa de la guerra civil y de la dictadura ilegítima que se produjo

deje ya eso del retintín del franquismo o los herederos de no sé qué porque primero es mentira se lo digo créame y además yo creo que no es un recurso

ni real ni verídico a la hora de hacer política usted ha defendido algo va a fracasar pero eso no es mi problema usted ha dicho que ya sabía por dónde iba a venir mi discurso y yo lo he asentado en lo que nos une el

esos son los elementos que yo he reivindicado elementos verdaderamente democráticos que han fundamentado cuarenta y tres años de

y de desarrollo económico sin precedentes en españa por eso mismo

que no utilice ese recurso facilón del franquismo

un poco más fino en esas cuestiones tratando de meternos a vox al partido popular ciudadanos en el mismo saco

que tiene que afinar un poco en ese sentido y además es que se trata de una propuesta de declaración

obsesionados con defender una república idílica que no existió una república idílica que no existió

porque esa república fracasó y nos llevó a los españoles a una guerra civil y a una dictadura ilegítima o sea ese es el elemento fundamental usted se olvida de esas cuestiones hay que hacer el análisis de por qué llegamos a ese sentido es decir es una época de nuestra historia que ha sido estudiada desde luego analizada en profundidad

todos los días nos enteramos de nuevas cuestiones más pueril resulta ese intento de determinadas fuerzas como la suya de presentarla

no precisamente paraísos perdidos defendemos realidades ganadas y actuales y consolidadas eso es lo que nosotros defendemos o sea que por eso

de esa manera tan simplona vuelvo a decir

ha visto usted la enmienda de totalidad del partido nacionalista vasco pues igual sale eso otra vez

del discurso que usted ha dicho no es ni siquiera se va a conmemorar la segundo república igual volvemos otra vez con la burra a brincos de nuevo

igual le viene bien además porque eso es lo que es el partido que usted representa la coalición el grupo que usted representa confusión división

y todos sus valores lamentables bueno que venga la autodeterminación de los nacionalistas división confusión enfrentamiento y para finalizar señora presidenta la señora agirre hablaba de la república vasca y que al nacer y vivir

eso lo respeta la constitución española lo ha desarrollado lo defiende y lo garantiza de hacer vivir

que usted quiere a mí no me permitiría vivir y morir en castellano y a muchos no les permitiría
nacer vivir y morir en castellano muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria agirre andrea zurea da hitza

pues yo tampoco sabía lo que iba a decir cada uno o no esperaba que algunas personas dijeran ciertas cosas como por ejemplo el señor hernández nunca hubiera pensado que nos acusase de sectarismo al

la cuestión es muy simple señor hernández nosotros respetamos su proyecto respeten ustedes el nuestro es una cuestión de física hay la misma distancia entre dos puntos a y b y b y a

no nos une la misma nación pero sí la misma clase y precisamente por la memoria que usted decía por el respeto a esos valores es por lo que luchamos tanto ustedes como nosotros por un futuro justo digno igualitario por la memoria de aquellas personas que dieron su vida por esos valores tampoco nos vamos a oponer a su propuesta tampoco nos opondremos a la

hablar como si estuviera en el congreso de los diputados en madrid sin tener en cuenta aquí las dos fuerzas mayoritarias elegidas por voluntad popular y luego lo que proponen es un oxímoron republicanizar la monarquía la república

y la monarquía que por definición es antidemocrática sin entrar a valorar luego la monarquía de la tribu aldea española ya sería otra cuestión que bueno también que ya hemos hablado recientemente pero bueno en su caso

o yo me he expresado mal no he hablado de política ficción he hablado de algo

en la facultad ya hace muchos años de la historia ficción del querer escribir lo que hubiera pasado si la historia es la que es entonces esos ejercicios usted los ha realizado qué hubiera pasado si

por todo lo demás bueno pues no esperaba menos en su respuesta pues posiblemente al hablar de valores

los valores ahí los defenderé a la señora de vox

pero no me ha parecido escucharle igual estoy yo despistado porque usted ha dicho

es el mismo tipo de violencia que lo que ha ocurrido al mitin de vox lo que no me ha parecido escucharle es que haya condenado ninguno de las dos yo le adelanto que mi partido condena otra las pintadas en todas las sedes y en cualquier lado y todo lo que sea un estorbo para la democracia todas y cada una de ellas señor barrio

espuelas para defenderse solo pero me ha molestado cuando usted ha dicho que

en democracia va a fracasar porque esta cámara votará sí o no la

la segundo república fracasó por un golpe militar que por cierto

yo no sé de dónde ha sacado usted que fue un golpe militar origen o fruto de la misma república no

mil novecientos treinta porque muchas veces cogemos la historia

de forma anecdótica y arrancamos en mil novecientos treinta y uno porque nos interesa pero vamos a ver cómo era la españa de mil novecientos treinta que igual es interesante hacer también ese ejercicio y lo voy a decir en palabras de dos intelectuales que pueden ser de todo menos de izquierdas primera

liberal sí pero desde luego de izquierdas no decía quince de noviembre de mil novecientos treinta esa españa anterior a la república somos nosotros

y nada revolucionarios quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos españoles vuestro estado no existe

pero vayamos más allá todavía vayamos un poquito más al margen a la derecha

usted sabe democristiano de pro y de izquierdas nada nada

después de seis años de dictadura qué quedó de españa todas las fuerzas legítimas rotas roto el ejército

rota la hacienda rota la justicia de cuyo rebajamiento ni el propio ministro de entonces puede tener completa idea

a dar mítines en los púlpitos todas las fuerzas legales rotas pero en cambio intactas todas las fuerzas viejas qué ha quedado

me fijaré en el centro al día siguiente todos los cacicatos estaban en pie

porque así nos interesa no no señores respeten también esa parte de la historia y no digan que el caos en el que vivía asumida una españa con una constitución de mil ochocientos setenta y seis que ya no se la creía ni el mismo rey

vamos a ver el caos no empezó en mil novecientos treinta y uno señor egibar señor hernández yo es que no quería seguir en este debate

cuando pase esta pesadilla de la pandemia y podamos volver a abrir las sociedades

pues discutimos sobre estas cuestiones de la historia yo creo que hoy lo realmente importante era eso subrayar los valores que había de fondo en todo esto

de poner orden en un estado absolutamente destruido y desestructurado

gracias al impulso de unos valores que son los valores del republicanismo del republicanismo cívico del que los socialistas hablamos tantas veces muchas gracias eskerrik asko

edo haien oinordekoena zergatik la república vasca confederada con las demás repúblicas ibéricas hau agirrek esandakoa da

ese es el mayor y mejor homenaje que podemos hacer a quienes inspiraron

aludimos que es la mejor inversión y conexión

creo que es un intento de actualizar para no quedarnos con una foto fija de hace noventa años y decir qué bonita

o qué sangrienta es por alguna de las vicisitudes que tuvo la república en su poco espacio de tiempo y que duró los cinco años

valores y subrayemos esos valores y eso es lo que nosotros hemos hecho en la enmienda

hori da guk esan duguna y creo que esto es hombre tiene su sentido y

de la lengua francesa y del euskera y menos mal que bueno pues que ha habido un diputado que ha impulsado

nacional francesa pero es que del mismo modo en nombre de la

también se suprimieron todos los derechos de los territorios vascos de iparralde que algunos creen que derechos históricos solamente ha habido en territorios de euskadi sur que no que también tenían derechos históricos propios y en nombre de la revolución

la mano de la república quedaron nunca mejor dicho guillotinados todos esos derechos

yo digo no la perspectiva de la república sí los valores y principios republicanos

individuales y colectivos y con los principios democráticos hori izan da gure ekarpena ez dakit asmatu dugun behintzat planteatzen

bueno señorías nuevamente vemos en este parlamento nostálgicos de la segunda república obsérvese además que ninguno de los aquí presentes la hemos vivido

y la democracia dentro de esa labor de propaganda para blanquear a un régimen sectario y liberticida que condujo a españa a una guerra civil

o llámese también ultraizquierda más bien nos la venden como una auténtica democracia asegurando que la monarquía actual no lo es creemos que el concepto

cuba china o corea del norte pero les voy a enumerar algunos derechos y libertades que hoy disfrutamos y que ustedes no han hecho alusión que además en la

libertad para criticar a cualquier institución del estado hoy lo tenemos por eso ustedes critican la monarquía en la segunda república no lo había libertad de información hoy en día

libertad de religión gracias a dios también la disfrutamos hoy en la

libertad de educación gozamos de ella hoy en la

y por último libertad para ondear la bandera rojigualda y en la segunda república esta bandera y la defensa de la monarquía estaban prohibidas señores de podemos

señor alonso no iba a entrar con usted pero le voy a responder vox rechaza todo tipo de violencia pero lo hace con la boca grande no con la pequeña y de soslayo como hacen ustedes condenamos todas las violencias incluso la de sestao vallecas y barcelona

vox no diferencia entre violencias como hacen ustedes

firmando un infame documento presentado por quienes instigan ese tipo de violencia los señores de podemos eskerrik asko

señora presidenta señorías miembros

señora consejera de sanidad bueno después de este curioso debate cuando menos sobre las esencias

vamos a hablar de las cosas de comer la moción que traigo hoy a este parlamento tiene origen en una interpelación que se le planteó al consejero de economía al señor azpiazu don pedro maría

relativa a los indicadores macroeconómicos sobre los cuales está establecido o se ha elaborado el presupuesto vaya por delante que desde un punto de vista económico yo creo que en esto deberíamos

y por parte del nuestro además siempre hemos extendido la mano pero creo que por parte del gobierno

aceptar muchas veces propuestas de la oposición y sobre todo

en el fondo esta moción solo se remite a tres cuestiones fundamentales que yo creo que es esencial que compartamos en primer lugar que en temas económicos haya transparencia se pide transparencia en segundo lugar que se respeten los procedimientos y que se respete este parlamento que se le tenga respeto a este parlamento vale que el gobierno tenga una mayoría muy cómoda

cosas distintas en la propuesta anterior de acuerdo que el gobierno tenga una mayoría muy cómoda

pero este es el parlamento esta es la cámara de representación de la voluntad de los ciudadanos que la han elegido y el parlamento debe ejercer una función de control y en tercer lugar la tercera cuestión que creo que es fundamental en temas económicos y yo creo que aquí podríamos estar los grupos o al menos la media de los grupos sustancialmente de acuerdo

son tres cosas tres patas para construir una relación por lo menos desde el punto de vista económico y que ayuda a toda la sociedad transparencia

y ayuda al sector productivo transparencia respeto a este parlamento y ayuda al sector productivo eso es lo que se pide no se pide más en la interpelación que le planteé antes de este receso

lo único que le venía yo a decir era que era conveniente revisar las macromagnitudes sobre las cuales se ha elaborado el presupuesto es que el gran problema que tenemos es que el presupuesto se ha elaborado sobre un dato de crecimiento que es que el propio gobierno ha reconocido que ya no va a ser tal claro si tú haces los presupuestos pensando que vas a crecer casi el nueve por ciento y de repente tú mismo lo corriges y dices no el seis coma siete en el mejor de los casos sobre esto también hablaremos pues hombre

revisar también las cuestiones presupuestarias y esta moción lo único que pretende es que cuando haya que realizar un ajuste presupuestario porque habrá que realizar un ajuste del gasto

sabemos el señor consejero y yo usted y yo lo sabemos usted y yo lo sabíamos y usted y yo lo sabemos habrá un ajuste será por la vía de derecho será por la vía de cuál es la vía de derecho pues habría que hacer unos cambios formales evidentemente

para la inyección de los fondos europeos que veremos a ver en qué queda

dejar de ejecutar partidas presupuestarias es un ajuste encubierto del presupuesto consejero no me diga que no hombre

entonces lo que se plantea simplemente en esta propuesta que insisto he intentado redactarla como

lo que he intentado proponer y lo que propongo a esta cámara simplemente es una cosa y es que cuando haya que hacer este ajuste porque habrá que hacerlo no haya que hacerlo fenomenal mejor para todos pero sí hay que hacer este ajuste que

de los de siempre que no nos olvidemos de los autónomos que no nos olvidemos del sector de la hostelería que no nos olvidemos

que no se reduzcan las partidas presupuestarias destinadas a impulsar la productividad que es

dinero para el gasto público y para los servicios sociales eso es lo que pretende esta propuesta ni más ni menos se ha intentado un acercamiento al gobierno de buena fe finalmente bueno agradezco la buena disposición

no ha podido ser también por cuestiones parlamentarias pues también porque había una frase

la propuesta dice que ante la necesidad de ajustar el gasto previsto en los presupuestos no se disminuyan las partidas destinadas a ayudar al sector productivo quiere decir no claro es que

de ajustar el gasto previsto en los presupuestos ojalá ojalá pero es que usted y yo lo sabemos que siempre pasa o sea pasa todos los años anteriores cuando insisto sistemáticamente se dejan de ejecutar ciertos porcentajes de las partidas presupuestarias y esto es marca de la casa esto se hace en la diputación foral de bizkaia

como cuando se dijo que había un remanente de mil millónes pero oiga el remanente de mil millónes que había en los presupuestos anteriores

entonces lo que hay que hacer es ajustar la partida presupuestaria a lo que es la previsión efectiva de gasto a lo que va a ser el gasto real porque es que si no no hay transparencia y si no

no puede ejercer su función de control al gobierno por eso yo les digo como segundo principio fundamental en cualquier relación económica que sería muy positiva que el gobierno

y traer aquí los datos y las previsiones con transparencia

el gobierno vasco hace una actualización del cuadro macroeconómico para euskadi y habla

más adelante le digo bueno yo creo que es incluso un poco generoso el seis coma siete pero bueno más adelante el seis de octubre dice bueno vamos a crecer un poco más el ocho coma nueve señor consejero están los principales indicadores económicos de instituciones privadas hablando de dos puntos menos al menos un punto y pico menos creo que es muy generoso no señor gordillo usted esas cosas

empezamos a discutir los presupuestos por cierto que siempre nos echan en cara que no quisimos

y no cogieron ni una ni una la única enmienda las dos únicas enmiendas que se aprobaron fueron una enmienda técnica de autocorrección suya del gobierno y otra enmienda relativa a una ayuda por el tema del sáhara

yo creo que de mil y pico enmiendas alguna habría buena pero bueno no pasa nada

le pregunto consejero el barril de brent está un poco inestable

no tiene importancia considero leo textualmente que las previsiones incluidas en los presupuestos siguen siendo válidas eso me lo dice el ocho de marzo una semana después

dice bueno habrá que corregir un poco a la baja esto este crecimiento que venimos diciendo del ocho coma seis

y entonces cuando le interpelo y mire eso se lo agradezco que por lo menos el dato lo diera aquí en este parlamento ese es el buen camino dar el dato aquí en este parlamento y no darlo luego fuera en una rueda de prensa yo

le reconozco las cosas cuando las hace en mi opinión convenientemente pero es que en general en esto no las está haciendo entonces el veintiséis de marzo ya hace el ajuste dice bueno veníamos diciendo que íbamos a crecer el ocho y pico ocho coma seis casi nueve pero no el seis coma siete una bajada de dos puntos eh tela si usted estuviera en la oposición como cuando era usted un excelente portavoz de economía por cierto en el congreso que eran diputados en el partido en el congreso cuando usted se vino aquí a ser consejero

es que hay que dar los argumentos y hay que dar los datos reales y esto

me encantaría que las previsiones electorales fueran estas a ver si así voy creando un estado de opinión

es que usted sabe que no funciona así los presupuestos de euskadi por tanto están basados en un cuadro macroeconómico repito con una previsión de crecimiento del ocho y pico

al menos dos puntos por debajo pues bien nosotros como oposición leal de verdad lo único que le pedimos en serio lo único que le pedimos es que haga los ajustes

por favor no perjudique al sector productivo porque del sector productivo siempre se acuerdan las administraciones públicas

tienen que pagar impuestos cuando tienen que pagar cotizaciones a la seguridad social cuando tienen que adelantar el iva de facturas impagadas

tela en españa es que hay que adelantar el iva de las facturas impagadas tela

las posibles ayudas que haya que ya hemos dicho que son escasas pero bueno pues son ayudas que por lo menos el ajuste que haya que hacer porque habrá que hacer ajuste

eso es lo que pedimos eso es lo que pedimos a mí lo que me preocupa sobre todo es eso es en términos generales la actitud respecto a este parlamento porque ojalá que la economía vaya bien y ojalá que podamos crecer

ojalá recuperáramos tres puntos pero es que no tiene pinta en las propias previsiones económicas trimestrales que acaban de actualizar ya lo van deslizando un poco bueno la situación un poco tal el tema del covid el tema de las vacunas también vamos un poquito lentos no va mejorando la cosa en este sentido

en el tema del covid seguimos igual introduzco el tema del covid el tema de las vacunaciones

pero se lo digo simplemente porque es cierto que en este cuadro en esta situación económica la mejor inyección de buenas noticias para la economía sería conseguir cuanto antes lo que se llama la inmunidad de grupo no por no llamarle inmunidad de rebaño que era antes el nombre

la situación del entorno económico pues tampoco es muy buena el barril de brent sigue inestable la confianza del consumidor tampoco es especialmente buena

y luego está el tema de los fondos europeos que bueno

yo creo que sí yo creo que sí yo entiendo que usted quiera llevarse bien con su socio político de gobierno y tal

vamos a ver cómo evoluciona la cuestión nosotros estaremos aquí muy vigilantes a lo que voy es que consejero y usted lo sabe si es que el caso es que usted lo sabe y el caso es que estamos de acuerdo esencialmente en esto la diferencia es que usted

así de manera artificial sin hacer nada pero bueno yo lo que creo es que en temas económicos lo fundamental es que haya confianza o que los agentes económicos tengan confianza y para eso es fundamental que haya transparencia

actualizamos a la baja actualizamos menos de lo que deberíamos actualizar las previsiones de crecimiento yo creo que eso manda un mensaje negativo me preocupa por tanto que me preocupan muchas cosas me preocupa que no se hayan dado ayudas directas en tiempo y forma a pesar de tener un remanente de mil millónes me preocupa la propia existencia del remanente porque insisto aunque usted y su equipo consejero sacan pecho por tener un remanente de mil millónes todos sabemos que eso es que son partidas que no se han ejecutado

mucho menos en otras ocasiones pero siempre hay un remanente importante consejero usted lo sabe esto por qué es bueno porque les gusta jugar con esto mandan ya el mensaje a todos los departamentos de que no gasten no gasten en absoluto el cien por ciento de que no ejecuten todo

porque eso está mal eso está mal porque eso sustrae el debate parlamentario y la función de control que tiene que realizar este parlamento que era el segundo principio que yo le decía junto con la transparencia

y para poder ejercer sus funciones pues tiene que contar con una información detallada que por cierto el día que se active la ponencia del reglamento a ver si se activa la ponencia del reglamento

pues nosotros introduciremos la necesidad de crear e implementar como tienen todos los parlamentos modernos una oficina de control presupuestario

sobre todo la cuestión de la incertidumbre me preocupa la incertidumbre me preocupa la incertidumbre que genera sobre todo el que

que con todos estos vaivenes señor azpiazu no estamos dando la suficiente seguridad jurídica y económica al sector productivo es verdad que esto yo se lo echo a usted en cara o sea no le hago responsable de esto evidentemente al cien por ciento hombre también tengo un poco de consideración no evidentemente aquí hay muchos factores que

hay otros factores del entorno internacional pero hombre yo creo que los factores que usted controla que sería dar una información fidedigna y permanentemente actualizada a este parlamento yo creo que eso sí que lo puede hacer

podríamos tener podríamos garantizar una mínima seguridad jurídica

y ya finalmente y con esto termino lo único que planteo yo a este parlamento y para lo que pido la confianza de esta cámara es

en la que solo se dice una cosa en esta moción este parlamento solo diría una cosa y es obligar al gobierno vasco a que si tiene que hacer un ajuste en el gasto a que si tienen que hacer un ajuste del gasto por favor que no cargue ese ajuste a las ayudas al sector productivo que no disminuya que no disminuya las ayudas al sector productivo que es el sector que genera riqueza

todos los servicios de nuestra comunidad muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

buenos días señoras y señores parlamentarios señor consejero bueno en primer lugar decir que

por la oportunidad que nos ofrece de debatir esta cuestión

asumir el marco teórico que usted nos presenta con su propuesta de hecho

que el gobierno diga que no asume la frase que usted ha mencionado como una frase muy fácil de asumir porque no me parece para nada asumir de hecho considero que va en contra de todos los paradigmas económicos que en estos momentos organismos internacionales nada nada

el fondo monetario internacional ya ha afirmado que desde luego el paradigma económico no pasa por aplicar recortes en situaciones de ajuste económico y usted nos plantea como si fuese una operación lógica que es básicamente

que a la vista de una crisis

a la vista de la falta de capacidad de recaudación teniendo en cuenta y teniendo presente la crisis económica los gobiernos tienen que recortar

nosotros no asumimos y nosotras ese paradigma de hecho

al gobierno al señor consejero y lo he afirmado aquí cuando hemos tenido oportunidad de discutir esta cuestión en más de una ocasión

que las previsiones y los datos de los que

en la que se nos presentó el borrador de presupuestos como usted mismo yo también lo hice pusimos encima de la mesa los datos que ya por aquel entonces

planteaba respecto a discordancias en los pronósticos que el gobierno vasco hacía de la economía y nosotros le

era un error claro efectivamente en eso estamos de acuerdo

de liderazgo de lo público que ahí es donde seguro que discrepamos

supone que si con los recursos de los que dispone el gobierno vía recaudación no es posible a la situación y al gasto público necesario para liderar la recuperación económica hace falta como lo están haciendo ya le digo en todos los países de nuestro entorno es necesario y a la vista también de la flexibilización del déficit es necesario endeudarse y es más nosotros cuando al gobierno vasco le achacábamos que considerábamos que no estaba haciéndolo adecuadamente porque las previsiones que venían

no se podía ligar la recuperación económica al sector privado lo que les decíamos era que era

exprimir hasta el límite la tasa de referencia incluso más allá porque es una tasa de referencia y el gobierno vasco nos contestaba que no

y que en principio a la vista de las circunstancias en el futuro si efectivamente esas previsiones no se cumplían y era necesario mayor gasto público nosotros ya desde el minuto cero considerábamos que lo era que era necesario mayor gasto público

la capacidad de gasto público vía endeudamiento por parte del gobierno vasco ahí es donde discrepábamos porque ustedes decían

las futuras generaciones sin ninguna duda y nosotros ahí incorporábamos el elemento de la reforma fiscal con lo que ustedes tampoco estaban de acuerdo nosotros decíamos que paralelamente a la virtualidad de endeudarse más y de

había que acompasar una reforma fiscal que nos permitiera disponer en un futuro de mayores herramientas para poder hacer frente a ese endeudamiento en el que hayamos incurrido y también para que no nos volviese a pillar el toro

sin capacidad y herramientas para recaudar más

por qué las previsiones de recaudación son las que son bien por la situación económica sin ninguna duda pero también porque durante muchos años el proyecto fiscal del gobierno vasco y de las diputaciones ha sido el que ha sido seguramente que si hubiese sido otro las previsiones de recaudación serían distintas

somos no podemos asumir el marco de que lo único que haya que garantizar en caso de

que haya por qué hacer ajustes presupuestarios y nos congratulamos de que el gobierno vasco pero tampoco queremos asumir como si esto fuese un juego de a ver quién tiene más preferencia el tener que dar mayor apoyo a determinados sectores concretos como usted dice refiriéndose al tejido productivo

que efectivamente hay que garantizar la capacidad de las pymes

de las medianas empresas por generar actividad económica pero tampoco

esto de sus palabras que los recortes se apliquen si acaso a otras partes del presupuesto del gobierno vasco a esas no pero

que a eso no se le aplique ningún ajuste pero a otras cosas sí

y también quienes le acompañan nos han venido acostumbrando a recortar que es todo lo que tiene con el estado social lo que ahora en plena pandemia nos ha servido para protegernos en términos comunitarios a la sociedad eso es lo que usted plantearía en caso de tener que decidir qué recortamos usted plantearía que eso es lo que hay que recortar pues lo siento mucho pero a mí esos juegos del hambre en el que hay que decidir entre lo malo y lo peor pues no no me parece adecuado cuando hay otras fórmulas y ya le digo

que lo que planteamos es una fórmula mágica muy sencilla y que no se corresponde

con los paradigmas económicos o con la teoría ortodoxa en términos económicos que es que endeudarse y sacar billetes pues sí es muy fácil ya sé que usted me ha venido a decir eso pero lo siento mucho que ahora mismo hasta el señor biden quiere poner en marcha un plan

y por qué lo hace por qué despliega como la unión europea una capacidad de fondos públicos

porque es consciente de que el sector privado es incapaz de sacarnos en estos momentos solo de la situación que vivimos no vuelven a los recortes

los ajustes presupuestarios no están en ese marco de incentivar la economía de propiciar que la economía se recupere

qué sectores son necesarios potenciar para que la productividad sea distinta para que el modelo de desarrollo sea diferente en eso están

o teóricamente debiesen estarlo de su pensamiento político usted sinceramente va creo con diez años de retraso está hablando

de lo que ya ha quedado claro y evidenciado que no es una fórmula que sea socialmente válida para mantener o permitir

sociedad justa y ya le digo yo le conmino a que

un elemento muy necesario y una herramienta fundamental que ya le hemos trasladado al gobierno y que esperamos que en su momento

acuerdo de gobierno entre el partido socialista y del pnv figura y además así nos lo han trasladado en algún momento incluso en la negociación presupuestaria que cuando llegue el momento de esas reformas fiscales

que tengan presente a nuestra formación política en esa negociación

fundamental no lo que usted está comentando aquí que usted aquí básicamente lo que pretende es que las formaciones políticas que sustentan al gobierno porque imagino que no esperaba

semejante atrocidad que sostuvieran que la salida de la crisis

se acompañe con ajustes presupuestarios pero que estos ajustes presupuestarios preferentemente no vayan dirigidos a los sectores que ustedes no quieren

a plantear ya le digo que viene con diez años de retraso esos son paradigmas que a día de hoy nadie asume nadie asume fíjese que no lo asume ni el consejero con el que yo tengo

económica y presupuestaria porque lo hemos discutido respecto a la capacidad de endeudamiento que creemos que es mayor respecto a las reformas fiscales que creemos que se podían haber hecho antes pero hasta eso el consejero

usted comprenderá en ningún caso vamos a poder votar a favor y de ahí viene

gracias presidenta consejero señorías buenos días

tanto el gobierno vasco como los grupos parlamentarios que sustentamos al gobierno basamos nuestra acción política en esta

en un programa de gobierno dos mil veinte dos mil veinticuatro que se basa en tres principios garantizar la salud de la ciudadanía reactivar la economía y el empleo y no dejar a nadie atrás en ninguno de los parámetros que definen a una sociedad cohesionada

del país en el área programática relativa a una gestión pública transparente y responsable el gobierno vasco en lo que hace referencia a la gestión de los recursos públicos cuyo desarrollo se establece en once iniciativas hay dos que tienen relación directa con su moción primero desarrollar la planificación económica y estratégica para afrontar los grandes retos de país y las tres transiciones globales la energético medioambiental la tecnológico

segunda proseguir con una política presupuestaria basada en la utilización rigurosa de los recursos públicos y la sostenibilidad de las finanzas públicas procurando el cumplimiento de los límites de déficit y deuda dentro de un marco flexible de adaptación

y al ciclo económico con el fin de garantizar las políticas sociales e incentivar la respuesta a la crisis económica y de empleo provocada por la pandemia

los socialistas vascos analizando el debate de su interpelación vista también su moción

consideramos que no hay caso en su propuesta a tenor de lo explicado por el propio consejero de economía y hacienda el pasado veintiséis de marzo

ni por la gestión económica y presupuestaria del gobierno ni por las acciones y políticas de ayudas del gobierno hacia los sectores más afectados por las medidas restrictivas implantadas

hacen previsiones que cambian en poco tiempo los principales organismos internacionales están presentando

y al menos otro alternativo más favorable o desfavorable en función de la rapidez y eficacia en el proceso de vacunación la revisión al alza de las previsiones para la economía mundial sugiere que las medidas adoptadas en el ámbito fiscal monetario y epidemiológico mejoran el escenario básico

casi generalizada y el gobierno vasco conocidas las cuentas del cuarto trimestre y las variables principales del entorno ha actualizado también sus previsiones para el periodo

tuvo su interpelación usted lo acaba de decir del pasado veintiséis de marzo es que le dio la oportunidad al consejero para explicarnos el nuevo cuadro macroeconómico para este bienio

ocho años para recuperar el producto interior bruto previo a la crisis

en tres años y desde el inicio de la legislatura hasta el día de hoy han sido numerosísimas las iniciativas los debates y las propuestas que se han aprobado en este parlamento

y los compromisos tanto del gobierno vasco como de los grupos que sustentamos al gobierno en septiembre de dos mil veinte respecto a los despidos masivos en empresas industriales de euskadi entre otras resoluciones instamos al gobierno vasco

y a implementar acciones que contribuyan a la mejora competitiva de las empresas tanto en el aspecto relativo a la mediación laboral como en el refuerzo de instrumentos que ayuden a acelerar

teniendo en cuenta además la posibilidad de activar los instrumentos financieros en vigor que garanticen el arraigo y el músculo financiero de la empresa la concertación de las políticas en la mesa de diálogo social también en septiembre en cuanto a las medidas urgentes a adoptar en las ayudas extraordinarias

entre otras medidas se insta al gobierno vasco a mantener las ayudas complementarias a los erte en las condiciones acordadas en la mesa de diálogo social en octubre de dos mil veinte y respecto a la iniciativa relativa a la creación de un protocolo integral

acordamos instar al gobierno vasco a continuar facilitando la reestructuración de empresas en dificultades a través del refuerzo del programa bideratu y el apoyo

para abordar las transiciones tecnológicas en las que estamos inmersos todo ello complementado con acciones que favorezcan la recolocación y el reciclaje de las personas afectadas también en octubre sobre la planificación del gobierno ante la grave situación que sufren los sectores del comercio del turismo y de la hostelería se aprueba en este parlamento el compromiso del gobierno vasco a mantener adecuar y a incrementar económicamente las líneas de ayudas puestas en marcha

a los sectores del turismo de la hostelería y del comercio y se insta también al gobierno a la puesta en marcha de nuevos programas que minimicen

en estos sectores en noviembre respecto al compromiso de impulsar el empleo de calidad decidimos que este era un eje prioritario para garantizar la salida de la crisis

justa instándose a la implicación de los sectores que participan en la recuperación y reconstrucción de euskadi

en la nueva estrategia de empleo dos mil veinte dos mil treinta también en noviembre y con relación a la concepción de un plan de competitividad de las empresas vascas exportadoras de productos

a la internacionalización y en cuanto al debate relativo a las consecuencias del cierre total del sector de la hostelería por el gobierno vasco

a actuar en el marco de la mesa interdepartamental e interinstitucional y abordar las medidas del plan de resistencia en turismo hostelería y comercio continuando también

diciembre de dos mil veinte sobre la modificación del programa financiero a pequeñas y medianas empresas individuales y profesionales autónomos para el año dos mil veinte

a pymes personas empresarias individuales y profesionales autónomos acuerdo además en el que ustedes participan y que se ha puesto ya en marcha a partir del nueve de marzo febrero dos mil veintiuno y con relación a la implementación de medidas de apoyo a los autónomos aprobamos instar a las instituciones competentes en cada materia

las ayudas necesarias para mitigar ese impacto del covid diecinueve con el objetivo de salvaguardar el mantenimiento de la actividad económica y laboral de los sectores profesionales afectados respecto a las acciones llevadas a cabo por el gobierno para ayudar a esos sectores más afectados por la crisis del dos mil veinte además de la aprobación del berpiztu del plan berpiztu hay un plan de ayudas económicas sociales y empresariales

se complementan los erte se establecieron líneas de financiación para empresas pymes y autónomos en los primeros cien días

el departamento de turismo comercio y consumo movilizó setenta millónes de euros duplicando su presupuesto para esos sectores del comercio

se han aprobado los presupuestos dos mil veintiuno con un programa covid de quinientos cuarenta y dos millónes de euros se ha aprobado

se ha publicado el programa de ayudas al mantenimiento del subsector de equipamiento personal del comercio minorista por importe de dieciséis

el plan de resistencia del departamento de turismo comercio y consumo puesto en marcha para ayudar a los sectores de hostelería comercio y turismo asciende ya a ciento siete millónes de euros sin olvidar programas como el emprendimiento que también están contando con ayudas

se ha establecido un plan de ayudas a empresas principalmente a pymes por importe de cuatrocientos treinta y tres millónes de euros que además de suponer ayudas a quienes están sufriendo las consecuencias de la pandemia pretende apoyar proyectos de investigación transformación digital internacionalización transición energética

por tanto si bien las previsiones de la economía vasca van adaptándose a una coyuntura de incertidumbre con correcciones en este caso a la baja para dos mil veintiuno

y no se prevé un periodo de recesión para la economía vasca y concluyo no habrá recuperación económica si no recuperamos la salud y mientras logramos esa prioridad

tanto los debates mantenidos en esta cámara con unos presupuestos dos mil veinte prepandemia como en los debates y acuerdos establecidos en este parlamento en dos mil veintiuno

que la preocupación y ocupación del gobierno vasco es la reactivación económica y el empleo ayudando a los sectores económicos más afectados por la pandemia

no más claro y me remito a los hechos gracias eskerrik asko corcuera andrea

zuhurtzia printzipioa modu mugatuan edo aplikatu zuela esan dezakegu hoy estamos ante una iniciativa del grupo

y que solamente busca el bien común un beneficio social que si bien podría parecer lógico obvia

mayor que el covid y es creer que el mercado lo arregla todo cuando las cosas vienen mal dadas la derecha siempre se acuerda de lo público

a un parón económico fruto de algo que ya no funcionaba un sistema caduco un sistema obsoleto

en el reparto de la riqueza lo está en el robo por el robo en el sálvese quien pueda

mejor y la verdad es que es curioso es curioso ver a los

del sector público cuanto más pequeño mejor para todos acudir a este acudir al sector público cuando la cosa no funciona a exigirle ayudas para un sistema que a todas luces hace aguas eta beraz zein da gakoa

en el propio debate presupuestario los datos muestran que lamentablemente la crisis sanitaria y sus consecuencias se van a alargar y por tanto deberíamos disponer de un presupuesto de una herramienta acorde con la realidad hau otsailean bertan

jaio ziren aurrekontuak y los datos

en este parlamento aprobaron los presupuestos a las previsiones que el propio gobierno ha hecho públicas

la previsión de crecimiento económico ha caído dos puntos en poco más de un mes se pone encima de la mesa una caída de dos puntos en el crecimiento económico de la comunidad autónoma

apaga y vámonos y a todo esto tenemos que sumarle no solo lo que dicen los gabinetes

los datos sanitarios el desempleo la necesidad de cobertura social creciente en muchas familias de nuestro entorno

como la lucha de los y las trabajadoras de tubacex y de otras muchas empresas de nuestro país el cierre de un montón de negocios el fiasco de euskaltel etcétera esa y no otra es la realidad de nuestra sociedad y de nuestra economía y ante esta realidad lo necesario no son parches

ni es salvar la situación ante una posible reducción de ingresos y quitar de aquí para poner allí sin tocar unas pocas partidas concretas el tiempo de los apaños pasó pasó hace muchísimo tiempo y no se puede decir

para seguir con las mismas recetas y no abordar la necesidad de ingresos extras como por ejemplo con la instauración de una tasa covid que hasta el mismísimo fondo monetario internacional está proponiendo

o no abordar de una vez por todas una reforma fiscal tan necesaria

hoy más que nunca es necesario abordar la cuestión de los ingresos fiscales porque señorías hay quien en esta pandemia ha ganado más mucho más incluso hay quien en esta pandemia se ha hecho rico miremos a los países más progresistas y dejemos de creer en ese modelo caduco de thatcher y reagan porque es mucho más antiguo que del dos mil ocho esto viene ya de los ochenta

a este país somos lo que somos pero podemos llegar a ser lo que las personas de este país quieran ser siempre que pensemos entre todos y todas como pueblo

no podemos mirar al país por parcelas e incidir solo en aquellas parcelas que más capacidad de influencia tienen o que puntualmente más presencia mediática aseguran

que requiere afrontar cambios de calado que den un vuelco a esta situación difícil horregatik ezinbestekoa da bizi dugun momentuaren benetako dimentsioaz

que este debate sea con los y las parlamentarias porque para tratar y preguntar al consejero

los plenos de control vale dejando esto a un lado y centrándome en el debate la pandemia ha trastocado

compartimos por tanto con ustedes la gravedad del momento vivimos una constante incertidumbre con una grave crisis a muchos niveles uno de ellos el económico

nos enfrentamos a olas a rebrotes que nos impiden avanzar al ritmo deseado porque mientras no logremos frenar los contagios y la pandemia no presente una evolución favorable la economía vasca

y su recuperación no será tan rápida como a todos y todas nos gustaría y precisamente

la tónica general está siendo la de rebajar el incremento esperado para dos mil veintiuno y elevar la previsión para dos mil veintidós es decir que parte del crecimiento que se esperaba para este año se traslade al próximo y son previsiones realizadas por estos organismos previsiones de marzo

de algunos grupos políticos de esta cámara quienes ya disponían de esta información incluso antes de cualquier rebrote o incluso antes de cualquier informe o previsión que realizan los principales organismos internacionales pero lo que este departamento de economía y hacienda

actual lo que ha hecho es revisar el cuadro macroeconómico para el ejercicio para el periodo veintiuno veintidós del que subyace un crecimiento del seis coma siete por ciento para el veintiuno

un crecimiento robusto pero como previsiones que son varían y cambian en función de numerosos factores y actores y más aún en una pandemia como la actual y esta revisión demuestra la capacidad

tiene cintura es flexible capacidad de acción y reacción

pero gracias al trabajo y al esfuerzo por un lado de las administraciones públicas y por otro de empresas y trabajadores y trabajadoras de toda la sociedad se está resistiendo

y con malas noticias también tenemos mucho que hacer sí tenemos que seguir progresando y reconstruyendo lo que esta terrible pandemia está destruyendo

desde el minuto uno ha estado apoyando con recursos presupuestarios y con líneas de ayudas especiales a todos los sectores económicos perjudicados y se seguirá respondiendo porque sabemos que todos los esfuerzos serán pocos para aliviar las cargas que se está soportando

indica que a pesar de que las caídas han sido históricas el empleo y el tejido empresarial están aguantando relativamente bien en todo caso

tenemos un punto de partida sólido y no es bueno pecar de optimismo y creo que

pero tampoco es bueno mantener una actitud tan crítica y tan pesimista conocen muy bien cuáles son las prioridades en el terreno que hoy y ahora nos ocupan

preservar nuestra economía y proteger a las y los trabajadores y sus puestos de trabajo conocen las fortalezas de nuestro tejido confiemos todas y todos en su potencial y en el futuro que nos espera como país recientemente la agencia de calificación de riesgo standard poors otorgaba a la deuda del gobierno vasco un sobresaliente

una mejor calificación que se justifica por la autonomía fiscal vasca que lo hace más resistente que españa y que permitirá que euskadi se recupere más rápido y en este sentido

euskadi registró una ejecución presupuestaria más sólida en dos mil veinte por tanto no es que lo diga solo este gobierno o el partido nacionalista vasco no lo digo solo yo lo dicen agencias como standard poors por tanto les agradecería que

que este gobierno ejecuta siempre históricamente más del noventa por ciento del presupuesto y esa es la marca de la casa decir y hacer en este caso cumpliendo y ejecutando el presupuesto como los datos nos avalan que a la vista de estos datos y conocidas las actuaciones y prioridades de este ejecutivo no entiendo el sentido de la iniciativa del grupo vasco

pero no lo que hoy nos presentan porque que quede claro que en ningún momento este gobierno se ha planteado reducir las partidas presupuestarias de hecho al máximo de la capacidad de endeudamiento de euskadi para precisamente hacer frente a todos los imprevistos y así poder ejecutar todo el gasto y la inversión proyectada

con total transparencia y con el debido respeto a este parlamento el gobierno vasco seguirá respondiendo a todas las necesidades y dificultades que se presenten

en este sentido he realizado el ejercicio de repasar algunas de las actuaciones emprendidas que aunque la lista es bastante larga y me excedería del tiempo trataré de resumirlas

en dos mil veinte para garantizar la solvencia de las empresas viables el presupuesto del dos mil veintiuno con un programa covid dotado de quinientos cuarenta y dos millónes de euros al que ustedes han dicho que no durante los próximos cinco años el gobierno vasco destinará mil cuatrocientos millónes a la transformación digital en euskadi

y ahí estaremos con nuestra estrategia más sesenta y ocho programas de ayudas para las pymes de euskadi

alimentaria en el sector del turismo en enero se dieron a conocer nuevas medidas de apoyo dotadas con veintiuno millónes de euros incluyendo como novedad a las agencias de viaje

las ayudas al comercio vía bono dendak dieciseis millónes de euros al sector del equipamiento personal del comercio minorista vasco ayudas que junto con los setenta millónes del plan de resistencia del dos mil veinte alcanzan ya la cifra de cien millónes de euros también los objetivos de formalización por programa aprobados por el consejo del instituto vasco de finanzas

cerca de ciento noventa y el pasado martes el consejo de gobierno ya ha autorizado al instituto vasco de finanzas la creación de la sociedad pública finkatze kapitala finkatuz para gestionar el fondo finkatuz

enajenación y gestión de participaciones financieras a largo plazo

para garantizar que mantengan su arraigo aquí y ejerzan un carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco con un capital

ayudas extraordinarias para empresas de inserción y creación centros especiales de empleo y también no nos olvidemos de los complementos a los erte prorrogados por este gobierno y podía seguir con más sectores

con por ejemplo las subvenciones de producciones profesionales de artes escénicas o las ayudas para impulsar

helburu komuna eta euskadi next es la respuesta vasca y es nuestra propia propuesta para optar al mecanismo al mrr de los fondos next generationeu

y una oportunidad para acelerar las tres grandes transformaciones de futuro tecnología energética y medioambiental demográfica y social tres transiciones globales

a todos los portavoces que ya sé que todos van a votar en contra me lo imaginaba

aquí la verdad es que en temas de economía prácticamente solo debatimos usted y yo

es que me sirve para reafirmarme aún más en lo que ya pensaba anteriormente y cualquier duda que pudiera tener

se me quedan automáticamente disipadas y disueltas aunque

señor azpiazu señores de los grupos que apoyan al gobierno yo creo que está de acuerdo en una cosa y es que los presupuestos se construyeron un poco sobre el cuento de la lechera sobre unas previsiones

pero es que se construyeron sobre unas previsiones de crecimiento que no han sido las reales en eso estamos de acuerdo la oposición en general en el tema de que aquí ustedes tiraron por lo alto en eso yo creo que la oposición puede estar en general de acuerdo luego cada uno tiene evidentemente su relato tiene sus propuestas y demás pero bueno aquí se repite siempre el mismo esquema señor soto usted y yo debatimos normalmente temas de economía bildu

más bien el tema vasco siempre se introduce y luego los grupos que apoyan al gobierno hacen de gobierno

pero claro es que la mimetización que tiene su grupo con el gobierno es tal es que creo que ya ni se dan cuenta porque es que ya usted cuando habla dice

nosotros siempre hemos tratado con el debido respeto al parlamento

es que la mimetización es tal es que además la propaganda

con la que nos inundan los grupos suyos es que es muy superior a la que hace el propio gobierno hoy me ha gustado mucho más

que lo que suele hacer es pues plantear más o menos un discurso que es el plan de gobierno más o menos actualizado con buenos datos y tal que la versión suya que vamos lo ha hecho mucho mejor la señora corcuera hoy señor azpiazu

no la trato como parlamentaria en fin volviendo al tema señor soto le digo una cosa desgraciadamente desgraciadamente se va a llevar usted una alegría que es una desgracia para nuestra economía

para pedir permiso no tienen más remedio que hacerlo para ampliar la deuda usted tranquilo que ya verá usted cómo se va a producir una ampliación de deuda la ampliación de la deuda no es un la existencia de la deuda

o no solo endeudarse sino directamente creación de masa monetaria dándole a la maquinita de hacer dinero y luego sobre todo cuando se está

esa deuda es ilegítima eso lo hemos oído muchas veces

de su partido muchas veces y como la deuda es ilegítima pues no hay que pagarla si se pierde la confianza en los mercados entonces ya la verdad es que la cosa degenera muchísimo

es primero llamar la atención al gobierno de la necesidad que tiene de no solamente actualizar sus previsiones

oiga es que en octubre en octubre del año pasado

que la previsión de crecimiento iba a ser cinco coma ocho cuando aquí el gobierno hablaba de casi el nueve el bbva ya decía cinco oiga no me diga pitonisa

y hacemos nuestra función que es controlar al gobierno y por lo visto controlar a los grupos que apoyan al gobierno

se ha convertido desgraciadamente esta labor parlamentaria por eso sintetizando y volviendo un poco a la idea inicial es una pena

por esta cuestión de apoyar al tejido productivo que más ha sufrido decía el señor soto y creo que también lo ha dicho la portavoz de bildu que hay otros sectores evidentemente pero hombre yo creo que el sector productivo lo ha pasado particularmente mal

lo que pretende es reconocer vayan ustedes ahora a los hosteleros a los autónomos vayan ahora al tejido empresarial que ha tirado de la poca tesorería que tenía que se ha endeudado que se han endeudado con sus bienes personales para sacar adelante las empresas y díganles que es que no votan porque es que el señor gordillo y es un poco liante dos mil quinientos millónes de deuda hemos metido en dos mil veintiuno meteremos un poco la previsión de recaudación del iva ha bajado casi un quince por ciento para dos mil veinte por cierto

con esta propuesta y con esto finalizo lo que se pretendía simplemente es poner en valor este parlamento y sobre todo poner en valor la necesidad

buenas otra vez señor gordillo fíjese si le han hecho caso

con respecto a uno de los tres puntos iniciales en su intervención uno de ellos era el de la transparencia que los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno han venido a hacer un ejercicio de transparencia nos han hecho una retahíla de programas

faltaría tiempo no falta tiempo para poder hablar de cada uno de ellos porque seguramente que matizaríamos muchas cosas respecto a muchos de ellos claro enumerar aquí doscientos programas con cifras económicas que ya le digo que hay que matizar pues en fin

estamos de acuerdo señor gordillo no solo nos reafirmamos en oposición también creo que en ocasiones puntuales

que desde luego no va a la cuestión de fondo respecto a la cuestión de fondo

precisamente cuando el gobierno vasco ya trajo una modificación de la ley de presupuestos de dos mil veinte y usted se extrañaba muchísimo porque nosotros

cuando tenía que ampliarse o se ampliaba la capacidad de endeudamiento del gobierno vasco para precisamente compensar la pérdida de recaudación del presupuesto o de la previsión que figuraba en el presupuesto del dos mil veinte no sé si se acordará nosotros precisamente

fue porque considerábamos que lo único que pretendía el gobierno vasco

equilibrar las cuentas es decir seguir manteniendo el mismo nivel de gasto que habían previsto en el presupuesto de dos mil veinte pese a que hubiese una pandemia

de unos millónes que se elevaba el presupuesto en esa modificación la cifra que nosotros considerábamos que era necesaria para una recuperación económica a la vista del peor momento histórico que se vivía en este país y teniendo en cuenta que estamos viendo ya digo en una pandemia ese debate se tuvo usted se sorprendió porque

más allá creíamos que no bastaba solo con equilibrar las cuentas con que una previsión de recaudación bajara y para poder sostener las cifras de previsión de recaudación nos endeudáramos para quedarnos en cómputo cero creíamos que en un momento

encontraremos con una modificación que aborde mayor

y no quiero ser un pitoniso en este caso pero seguro que nos volveremos a abstener porque seguro que volverá a simplemente incidir

nada más respecto a algunas puntualizaciones que se decían algunas puntualizaciones algunas de las cosas que se decían por parte de la señora

de economía y se presentó el borrador de presupuestos ya se mencionó aquí por parte de varios grupos

que hablaban de datos discordantes respecto a las previsiones que hacía el gobierno vasco y las previsiones que hacían ellos y ellas y no eran los únicos y esos datos también los tenía el gobierno vasco supongo que tendría incluso mejores

los datos que diesen la previsión de datos que diesen no nosotros los organismos que le estoy nombrando

pensar que tendría mejores pero quiso poner esas cifras de previsión que no eran reales

a la vista de los sucesivos cambios progresivos que se han ido dando en las previsiones económicas del gobierno vasco y sí creemos que probablemente nos vayamos a mayor endeudamiento

o que se dieron vayan a peor porque ahora mismo uno de los elementos que sostienen también la economía

un escudo social planteado y puesto en marcha por el gobierno de coalición del estado cuando

la previsión económica que nos pone encima de la mesa el gobierno vasco en cualquier caso ya le digo creemos que el posicionamiento de fondo entre su formación política y la nuestra es diametralmente opuesto

que a usted le lleva a pensar que el endeudamiento después hay que pagarlo y que eso el endeudamiento no redunda en un crecimiento económico y en una recuperación

nosotros planteamos que en base al endeudamiento hay una recuperación económica del sector productivo porque

a que haya una estabilización de la economía y que a posteriori esa estabilización de la economía permita de hecho mayor recaudación

la estructura fiscal sea la adecuada usted dice no nos endeudamos y luego ese dinero va a haber que pagarlo y qué el endeudamiento no produce nada positivo nada automáticamente un planteamiento negativo el endeudarse es que yo me parece que es ya le digo un paradigma absolutamente erróneo y que no están en esas ahora mismo

que nada tienen de soviet ni de nada social comunista ni mucho menos sino que son organismos que de hecho en muchas ocasiones mantienen posiciones absolutamente neoliberales como la suya

usted ha querido llevar la circunstancia del cambio en las previsiones económicas presupuestarias al ámbito de la confrontación política sobre los presupuestos unos presupuestos que su grupo parlamentario no quiso negociar se basaron

porque consideraban que ya había un acuerdo presupuestario con otro grupo parlamentario cosa que ni había sucedido ni sucedió su enmienda a la totalidad de los presupuestos no prosperó y le recuerdo que era una enmienda idéntica a la que se había presentado para el ejercicio dos mil veinte cuando ni siquiera

la posibilidad de una pandemia así que de adaptaciones a realidades desde luego no nos van a poder dar lecciones ni siquiera plantearon en sus enmiendas parciales

la hostelería ni siquiera eso la aplicación de herramientas económicas de nuestro gobierno acompañadas además de las decisiones proactivas de europa y españa para resistir la pandemia y reactivar la economía y el empleo en los países que han sido más afectados por esa crisis sanitaria

en euskadi a la situación y eso no se nos puede olvidar pero tampoco se nos puede olvidar que han existido unas cuentas públicas

que han mantenido la actividad económica y el empleo con políticas que han sido alineadas con el gobierno de españa y también con europa no se nos olvide y hoy en euskadi para intervenir

adaptados a una situación de pandemia nos gustará más o nos gustará menos pero esos presupuestos están adaptados están hechos en una situación de pandemia y esto nos permite acudir

de endeudamiento nos permite además contar con la adicionalidad en los presupuestos de los fondos europeos y con el compromiso además de una gestión por parte del gobierno vasco de una gestión prudente de una gestión rigurosa y además responsable de esos presupuestos

están perfectamente identificados por el gobierno el gobierno tiene una hoja de ruta clara establecida a través de su programa de gestión a través del programa berpiztu y a través del euskadi next para que en conjunto la economía resista

de esa pandemia yo permítame que cuando

los tres parámetros sobre los que basaba su moción la transparencia el respeto al procedimiento al parlamento y la necesidad de ayudar a los sectores productivos en eso

se está haciendo por parte de los grupos parlamentarios al menos por parte de los socialistas vascos y también por parte del gobierno que envía la información que tenemos la posibilidad incluso de contrastarla con el gobierno y que además

al menos que hayamos oído que se ha decidido ir contra los sectores productivos no ha habido caso por lo tanto me vuelvo a reiterar para

y desde luego estamos convencidos los socialistas de que la mejor respuesta y la mejor solución

que tiene la ciudadanía desde luego es alinear políticas sería francamente incomprensible que en un momento de crisis en un momento grave de crisis sanitaria y económica

entonces yo sí haría valer algo que usted no ha hecho y es

si europa comenzó con esta pandemia con políticas de incentivo y de estímulo a la economía de los países que se habían visto más afectados por la propia pandemia que venga usted hoy en el sentido a plantear una moción en el sentido contrario a lo que la propia europa

no me parece tampoco muy de recibo y permítamelo que se lo diga eran necesarios los estímulos y los incentivos como ha hecho europa no los ajustes como ocurrió en el año dos mil ocho y yo creo que para finalizar yo creo que lo que ha conseguido señor gordillo con su iniciativa hoy

de las posiciones de todos los grupos de esta cámara con respecto a nuestra posición en los presupuestos eso lo ha conseguido yo no sé si eso le satisface más

que haya un absoluto inmovilismo en las posiciones que planteamos todos los grupos respecto a los presupuestos de dos mil veintiuno eso lo ha conseguido gracias

eskerrik asko presidente andrea señor gordillo le decía la señora

frase lo que ella consideraba que había conseguido que era que cada grupo nos enrocáramos

diez minutos de publirreportaje porque se lo ha dicho el señor soto han puesto encima de la mesa todo pero mire casualidad y esto es cierto como que me llamo leire ayer mismo me decía una persona llevo tres meses esperando el complemento de erte del gobierno vasco tres meses para alguno será peccata minuta probablemente porque

frases y de todas estas grandes propuestas que muchas de ellas estoy segura de que pueden servir y sirven

sus problemas y sus efectos en las personas más allá de lo que se nos dice y se nos vende señor gordillo usted y yo todavía no habíamos debatido ya nos iremos conociendo no se preocupe

pero estando de acuerdo con usted en una cuestión que creo que era

subyacía en su propuesta los presupuestos nacieron

una de las cuestiones que no me ha permitido apoyar

su propuesta que me diga que ante la necesidad de ajustar el gasto

porque es que eso no lo vamos a respaldar desde eh bildu bajo ningún concepto porque llevamos años años defendiendo otro tipo de política presupuestaria mire ahora

que ha pasado un siglo pero no ha pasado tanto tiempo el gobierno no se ha planteado en ningún momento hacer ajustes ni reducir partidas presupuestarias

cuando en las anteriores en la anterior legislatura incluso en la previa

en este país veníamos con propuestas de insuflar oxígeno a la economía y nos decían que no tocaba porque las políticas a aplicar eran las austericidas

con que las políticas austericidas eran un error a usted todavía le queda un poquito de camino pero seguramente

empieza a dar señales de vida inteligente pues quizás podemos hablar de eso y de la fiscalidad usted ha acabado diciendo muy poquita cosa

y lo mismo le digo de la deuda que también ha salido el tema y es que podemos estar aquí hablando un montón de tiempo sobre este tema que me parece apasionante pero es que

es que estemos con políticas fiscales casi casi previas a la anterior crisis porque lo que se hizo en la anterior crisis fue una pequeña un pequeño barniz y poquito más en una situación económica y social

audaces y no se están dando y no se están dando y se siguen negando cuando aquí se planteó por parte de eh bildu cuestiones de esas y por parte de otros grupos se niega la mayor

como ahora con el austericidio diez años más tarde diciendo hemos descubierto la panacea

igual hay demasiada gente que se ha quedado por el camino lamentablemente y también lo que usted había puesto encima de la mesa el tejido productivo estoy de acuerdo con usted el tejido productivo es fundamental en este país claro que lo es

que están en la calle ya muchos de ellos hoy mismo con la carta de despido encima de la mesa toda esa gente también es importante y los comercios

lo que está contemplado en este presupuesto per se per se va a ayudar lo que usted implica

lo siento pero no eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak

ya sé que la señora corcuera me va ganando pero qué le vamos a hacer centrándome nuestras cuentas presentaban antes de esta pandemia una solidez envidiable con el menor endeudamiento de todo el estado español y con superávit desde el dos mil diecisiete la pandemia nos coge con unas cuentas saneadas

en este último año pero como todo ha habido mucho vaivén y precisamente en función de la evolución de la economía y con las cifras e informes disponibles en cada momento

y sobre esa base se elaboraron unos presupuestos para dos mil veintiuno de doce mil cuatrocientos cuarenta y dos millónes de euros presupuestos reales

ni nada cifras reales proyectos reales hechos contantes y cifras contantes y sonantes como parlamentaria del partido nacionalista vasco vengo a defender lo que lo que esta moción exige

vengo a justificar el apoyo al tejido empresarial e industrial que mantiene este gobierno y que este grupo parlamentario siempre apoyará

miremos al pasado la industrialización

por tanto aquí vengo a defender lo que esa moción exige que ya estamos haciendo y que quede claro que en ningún momento

del grupo popular vasco ciudadanos este gobierno en ningún momento se ha planteado reducir estas partidas presupuestarias de hecho y tal y como he dicho en mi primera intervención se recurrirá al máximo de la capacidad de endeudamiento

ejecutar todo el gasto y la inversión proyectada y para reforzar la capacidad de actuación

que permitirá al gobierno vasco reforzar su sólida situación financiera y disponer de más recursos a futuro sin olvidarnos que la emisión de noviembre fue reconocida internacionalmente con dos premios insisto

seguirá respondiendo a todas las necesidades y dificultades que se presenten con los instrumentos que ya están en marcha y los que en el futuro se arbitrarán y en adición a las comentadas en mi primera intervención no me gustaría dejar de citar por la relevancia que tiene en este debate de hoy las inversiones contempladas en las zonas de actuación preferente un plan

de inversión de ciento ochenta millónes de euros para dinamizar una veintena de proyectos tractores en comarcas desfavorecidas o zonas de actuación preferente de meatzaldea

desde los departamentos del gobierno estamos convencidos que este impulso adicional será definitivo para transformar a las comarcas más

lo indicado en mi primera intervención y como pueden observar como lo que acabo de citar

tiene identificados los ámbitos estratégicos de este país y han trabajado intensamente con otras instituciones vascas y con el tejido económico y social vasco nuestra ruta

y en la reconstrucción económica una apuesta de país pondremos todos los recursos necesarios y todo nuestro esfuerzo para salir adelante más reforzados

buenos días señorías después de muchos meses de pandemia de una gestión

de enorme y evidente frustración ciudadana la inmensa mayoría de los españoles vuelcan todas sus esperanzas en la vacunación en esas vacunas que llegan con cuentagotas algunas bajo la sombra de la duda y dosis que la mayoría de nosotros desconocemos cómo y sobre todo cuando

estamos viendo ya cómo hay dos tipos de personas las que están vacunadas y las que no

y no se sabe si recibirán la segunda si esa segunda dosis será de otra marca si deberán conformarse con la inmunidad que proporciona esa primera dosis pero básicamente hay dos vacunados y no vacunados

estar vacunado o no pero que va a suceder en el ámbito laboral

raza lo que pretendemos con esta proposición no de ley es prohibir la difusión de listas de personas vacunadas o lo que es lo mismo no vacunadas un paso necesario para impedir este tipo de información y que esto se convierta además en una herramienta de discriminación laboral algo no solo reprobable sino absolutamente ilegal tenemos un precedente

aunque ello supusiera vulnerar los más elementales principios de la ley oficial de protección de datos en vigor en nuestro país

pero el riesgo de discriminación laboral es una realidad irrefutable tenemos un ejemplo

del personal también de centros educativos que por los motivos que sea haya declinado vacunarse condiciona esta circunstancia su ubicación

permite la ley que así suceda y qué sucede con trabajadores considerados esenciales que hayan descartado vacunarse que solo hayan recibido una dosis de astrazeneca o que aún no hayan tenido acceso a la vacuna nos consta que estar

en algunos centros sociosanitarios privados algo absolutamente ilegal además de carente de toda lógica porque la vacuna

solo los efectos más graves de la enfermedad pero estas cosas suceden y ya hemos visto y oído muchas noticias en las que se referían a un trabajador no vacunado como el causante de una cadena de contagios en una residencia vacunada cuando todos sabemos que el asunto no funciona así

sospecha la culpa ya ha sido vertida sobre el trabajador en cuestión

esto también deberíamos evitarlo también es una práctica contra la que deberíamos luchar especialmente en un momento en el que la vacunación no solo es una elección sino que fundamentalmente de la disponibilidad de dosis y de la gestión de las administraciones de cada uno de los diecisiete protocolos de vacunación existentes dicho esto parece claro que estar vacunado o no

el empleado que opta a un determinado puesto de trabajo es un comportamiento humano aprovecharse de las circunstancias en beneficio propio que es mejor que evitar esto

no de ley en este sentido es preciso tener muy en cuenta varias cuestiones

es algo que decide cada persona de hecho en las sucesivas campañas de vacunación contra la gripe el porcentaje de personas vacunadas apenas supera el sesenta por ciento

y que siempre han sido además vacunas contrastadas además crece la desconfianza gracias a los vaivenes

amplificadas por autoridades sanitarias y no sanitarias empeñadas en lanzar a la población mensajes contradictorios en las circunstancias actuales

aunque ese fuera su deseo son muchos miles de personas que han de esperar a que la administración decida cuándo es su turno que han de esperar a que existan vacunas para inocularles y es responsabilidad además de la administración velar por el cumplimiento de la ley también garantizar la no discriminación repito de cualquier persona por razones de sexo raza o edad

y uso de listas de vacunados que actuar una vez se hayan utilizado y todas las personas aquí presentes sabemos que si no ponemos los medios necesarios la información

va a repercutir en la empleabilidad o no de las personas es ilegal preguntar a un candidato a un puesto de trabajo si está vacunado o no es una información que no debería incluirse en un currículum vitae

esta pandemia está cambiando muchas cosas y están sucediendo además por imposición de los hechos

ni debate ni discusión de ningún tipo está cambiando y cada vez es más impositiva y menos democrática y están cambiando también las relaciones con las empresas

en serio riesgo además de desaparición la realidad hoy es bien distinta a la de hace algo más de un año las necesidades y las exigencias también y podríamos también hablar de ese tremendo despropósito que suponen las diferentes campañas de vacunación en curso

de esos titulares sobre efectos adversos de los discursos políticos irresponsables de la disparidad de opiniones entre líderes y entre expertos

exigen confianza en una población que cada vez desconfía más dicho esto insisto la decisión de ponerse o no la vacuna debe ser

alguna tampoco laboral y esto es especialmente importante en el sector sociosanitario uno de los más expuestos al virus allí donde cualquier

la vulnerabilidad de las personas mayores sea tenida en cuenta vacunado podría ser considerado como una condición necesaria para el acceso a un puesto de trabajo

así vuelvan a producirse para provocar un debate que no se está produciendo y que además es absolutamente necesario queremos saber

y sobre todo de las que sostienen al gobierno y no tienen reparo alguno en descartar cualquier aportación del resto de representantes parlamentarios para imponer la suya

y hoy pedimos que a los grupos con representación en esta cámara apoyen una moción en la que considero que podemos estar todos mínimamente de acuerdo queremos escuchar alternativas queremos discutirlas queremos hacer algo que necesita nuestra sociedad

de todos se convierta también en una herramienta para la discriminación el pasado fin de semana escuchamos al presidente del gobierno vestido de candidato a la asamblea de madrid clamar

vacunar vacunar y vacunar y yo le preguntaría qué es decidir no vacunarse qué es vivir sin vacuna porque estás de los últimos en la lista señor sánchez identificar vacuna con libertad es también lo contrario negar

y esas razones pueden ser la inoperancia de una administración que ha demostrado escasa eficacia y aún menos efectividad

las libertades que la carta magna reconoce a todas las personas obliga a respetar la legalidad en vigor y a acordar medidas cuando haya un riesgo real de incumplimiento de la ley cuando haya evidencias de que se está incumpliendo

no ocurra para que estar o no vacunado no sea causa de discriminación de ningún tipo ni social ni laboral eskerrik asko

bien se presenta ante este parlamento una proposición no de ley

es de gran interés y de una cuestión que no solamente entiendo que se habrá debatido se debate en comisión según lo que he podido seguir sino que ha sido

de llevar a cabo o de gestionar los procesos de vacunación desde el punto de vista también de lo que son

lo que establece es el reconocimiento de una obligación legal que ya existe que es prohibir el uso de distribución y propagación de listas de personas que estén vacunadas el tema de la vacunación ha suscitado siempre en todas las sociedades modernas

es conocido en ciertos países debates de ciertos grupos antivacunas

para forrarse a costa de la salud de las personas que las vacunas son también

del gobierno incluso casi de controlarte o de insertarte algunos tipos de virus para luego tenerte controlado y tal esto desgraciadamente no me lo estoy inventando sino que son realidades

y desde las sanidades públicas no obstante desde un punto de vista

pues sí que se plantean evidentemente o se pueden plantear en mi opinión dos tipos de cuestiones esencialmente la primera es si existe el derecho a negarse a recibir una vacunación y la segunda

incluso publicándolos creando casi casi pues listas de la vergüenza del que no se quiera vacunar si esa es la opinión mayoritaria en cuanto a lo que se refiere

los sistemas constitucionales acaban reconociendo lo que pasa es que claro esto puede llevar a establecer una especie casi

una excusa para poder cerrar o para poder limitar ciertas prestaciones o la participación de estas personas en ciertas actividades y es aquí donde está el debate

hay unas cuestiones que afectan a menores que eso sí que la jurisprudencia como ustedes ya saben también puede en momentos determinados llegar a intervenir pero en principio son los padres también los que deciden en términos generales

debemos los representantes públicos debemos mandar un mensaje en positivo a la población de que hay que vacunarse y sobre todo responder a los poderes públicos garantizar pues que las vacunas efectivamente reúnen todas las condiciones adecuadas para ser administradas

europa en general lo cierto es que el proceso de vacunación en europa está siendo muy lento la sanidad pública está demostrando

un gran reto que es conseguir procesos de vacunación muchísimo más rápidos porque como se ha dicho antes en otros debates también

en la recuperación de la economía y la recuperación de una cierta normalidad social que también es muy necesaria y esto tiene además consecuencias en la propia psicología y en propias enfermedades o afecciones que tienen un carácter

en mi opinión con muy buen acierto por tanto yo creo que esto sí que desde el punto de vista público de los representantes públicos tenemos que reivindicar la necesidad

y que es necesario lograr esa inmunidad de grupo para garantizar la seguridad de todos dicho lo cual el problema o la cuestión fundamental que se plantea en esta proposición de ley establece insisto una cuestión que aunque no salga adelante la proposición que hoy presenta la señora martínez

por cómo suelen ser las aritméticas parlamentarias casi me atrevería

no sé si seré muy pitoniso pero casi casi le podría yo

en todo caso más acertado que lo de la previsión de crecimiento económico de nuestro gobierno

pero aunque no salga adelante eso no implica que el gobierno y las administraciones públicas carezcan de la obligación que usted ha puesto aquí por escrito la van a seguir teniendo porque en función de la propia constitución española concretamente en el artículo dieciocho punto cuatro que es el que establece en

la legislación orgánica que se acaba de reformar el reglamento sobre protección de datos personales ya establece el ilícito ya establece que es ilícito el establecer este tipo de se pueden establecer este tipo de listados porque evidentemente la sanidad pública tendría que contar con el listado quién se ha vacunado quién no para ir administrando el proceso pero lo que no se puede hacer es ni publicarlos

y de segunda etcétera etcétera y por lo tanto ya le digo aunque no salga adelante

sí que está garantizado su cumplimiento está garantizado además su cumplimiento y

a sanciones no solo de tipo administrativo sino incluso de tipo penal por tanto evidentemente evidentemente que la distribución y propagación de las listas de vacunados por covid diecinueve o por cualquier otra otro tipo de vacunas es evidentemente ilegal

constitución española por tanto nosotros avanzamos que votaremos positivo le leo la propuesta suya que además es sencilla de leer el pleno del parlamento vasco insta al gobierno vasco a prohibir el uso distribución y propagación de listas de vacunados

votaremos a favor por congruencia porque incluso los grupos que voten en contra no tendrán más remedio que respetar esto porque esto son normas son normas constitucionales

y son normas también por qué no decirlo internacionales muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemosek ez du hitzik hartu behar

gracias señora presidenta me ha sorprendido que no intervenga ninguno como habitualmente hacen pero bueno debe ser que están hoy muy cansados para ello

antes de esta larga semana santa inhábil debatimos aquí una proposición de bildu para entre otras cosas la elaboración urgente de un programa de vacunación en euskadi clara precisa y pública como todas las anteriores presentadas por los grupos de la oposición no salió adelante todo dentro de lo normal hasta aquí que este gobierno que se dice del diálogo y del acuerdo es una mezcla de martillo pilón y rodillo es algo obvio lo sorprendente es que ninguno de ustedes se sonrojó ni siquiera un poco

vox trajo a esta cámara una proposición muy similar con idénticos objetivos

intención de que el país vasco salga de la cola de españa en porcentajes de vacunación

de lo que le depara el futuro que el gobierno vasco acabe con los vaivenes que entre otras cosas están generando la gran desconfianza entre la población

cuando intervino en la propuesta de bildu y no en la nuestra qué demócratas

representantes del pnv y este partido que va a madrid a repartir clases de democracia

y bildu estas personas que hace escasos días reconocían y alababan públicamente al fundador de eta

y para colmo votaron en contra de lo que semanas después ellos trajeron y apoyaron esto es increíble es una actitud manifiestamente

es un fraude para todas las personas que con su voto configuraron este parlamento vasco un fraude para sus propios votantes muchos de ellos interesados en que en esta cámara ustedes rebatan las propuestas del malo o mala oficial que en este caso es la parlamentaria de vox

actuación de cara a su galería marcar perfil como si estuviéramos en campaña electoral dar la espalda a los intereses de la población de la que les votó y de la que no

la penosa gestión de los gobiernos vasco y español y el cansino ritmo de la campaña de vacunación en la que hemos depositado todas nuestras esperanzas de verdad creen ustedes que el hecho de que sea vox el partido que propone prohibir las listas de vacunados contra el covid diecinueve

en serio me lo dicen no señores y señoras en ningún caso solo demuestra que ustedes juegan a ser políticos y que rechazan hacer política esta misma semana hemos tenido la oportunidad de leer al goebbels del supremacismo progresista

maestre reclamando una vez más el control informativo para que los medios callen a más de tres millónes de personas

las últimas contiendas electorales han depositado su voto en vox democracia

hoy una vez más este parlamento vasco que está demostrando una preocupante inutilidad va a dar la espalda a una propuesta por el mero hecho de ser de vox da igual si es buena o es mala da igual si es necesaria o no da igual si va a dar rienda suelta a quien dudaba si utilizar o no la vacunación en su propio beneficio

bajas el trabajador que vaya a utilizar su condición de vacunado como ventaja en la competencia para lograr un puesto de trabajo esto es lo que hay y nada más y aquí no hay fascismo ni progresismo ni izquierda ni derecha

manifiestamente antidemocrático cuya única consecuencia

tarde o temprano alguno de ustedes traerá a este parlamento alguna iniciativa en este mismo sentido todos ustedes tendrán que lamentar además no haber actuado para prevenir la discriminación laboral de personas por el hecho circunstancial de no estar vacunados absolutamente lamentable lo que gracias a ustedes sucede en esta cámara

como parlamentario como constitucionalista y como persona este cordón sanitario que la mayoría de los grupos parlamentarios de esta cámara le ha puesto a uno de los grupos que ha participado

que ha participado en un proceso electoral y que ha sacado un parlamentario en este caso una parlamentaria por la circunscripción de vitoria este cordón sanitario que han impuesto ustedes aquí decidiendo quiénes son buenos y quiénes son malos pero qué se han creído tenemos un grupo parlamentario que no ha condenado la violencia de eta todavía y se van de cena con ellos algunos

nosotros tampoco todavía y resulta que a la señora martínez

ya no el feo la descortesía parlamentaria ya no el vacío

simplemente por el partido al que ella pertenece

a mí no me gusta la mayoría de las ideas que defiende la señora martínez es que no me gustan tenemos

en materia de economía en materia de distribución territorial del poder incluso en materia política casi de interpretación histórica pero

qué pasa el valor del diálogo y la confrontación de ideas eso no es un valor republicano vengan aquí me encantaría ver cómo el grupo parlamentario socialista de verdad

en madrid que ahora están de campaña electoral o en cualquier otra comunidad autónoma de españa que le están haciendo el vacío mira qué majos somos que estamos señalando a estos que son muy malos

cómo justifican eso incluso ante sus propios votantes gordillo jauna gordillo jauna